suman días a su vida pero no suman vida a sus días

y no están pensando en hacerlo mejor de hecho están haciéndolo peor están regulando vidas peores

euskal herria bildu no sube hoy a esta tribuna a buscar culpables de lo ocurrido pero tampoco vamos a permitir que

en la medida de lo posible se debe reducir al mínimo el número de trabajadores en contacto directo con un residente afectado por un posible caso

errotik moztu zuten erakundeek y a este respecto quiero compartir una preocupación con vosotras relacionada con qué podemos considerar una vida digna una vida digna que merezca la pena ser vivida es una preocupación que me generan algunas imágenes de eso que se ha denominado nueva normalidad me refiero a las imágenes de la nueva normalidad en los centros residenciales imágenes de aislamiento casi absoluto y contactos

pero a qué precio a precio de negarles la posibilidad de continuar con su proyecto de vida

tengo la impresión de que muchas de las medidas de esta nueva normalidad tienen que ver más con la seguridad de los gobernantes que con la seguridad de quienes residen en un centro

como nos recomendaban para evitar los contagios no sabíamos lo que iba a durar esto y enseguida vimos que había residentes que no iban a poder soportarlo

por ejemplo dejó de comer y de moverse se pasaba las horas mirando por la ventana había otros residentes que se quejaban y trataban de salir de los cuartos y la verdad es que ha sido muy doloroso tener que mantenerlos encerrados

yo tenía miedo de que se dejase morir y empecé a sacarle cada día un rato para ver si recuperaba las ganas y empezó a comer

hasta que un día vinieron los de atención primaria justo cuando la teníamos fuera y me dijeron que era un inconsciente y estaba poniendo en peligro a todo el mundo

ella dejó de comer otra vez y a los pocos días se murió yo no digo que no se fuese a morir igualmente que no quiso pasar por eso cuando devolvió el equipo de primaria

no nos digas eso se quedaron bastante tocados nos ha pasado a todos lo mismo

sin pensar lo que eso significaba para ellos gauza bat

behar dugu osasun sailburuak irailaren hogeita bian aurkeztutako protocolo para la vigilancia y el control de covid

y estas abdican a su vez en favor de los centros y aquí se encuentra el problema porque el problema es que al frente de estos centros rara vez encontramos una empleada o un empleado pública y sí

hasi gaitezen orain eta hemen neurri horiekin que el número de personas fallecidas en nuestros centros residenciales

no significa que no hayamos fracasado su trágico protagonismo en la pandemia

hacía el editorial de unos principales medios de comunicación de nuestro país una reflexión

esto no es un reproche es una autocrítica comunitaria hemos propiciado debates necios en vez de concentrarnos en temas importantes como este por diversas razones no hemos logrado poner residencias en la agenda política de este país aquellos que han actuado bien en algunos casos con grandes sacrificios lo mismo entre familiares que entre trabajadores o gestores

ese orgullo tan presente entre las profesionales esenciales ha permitido llegar hasta aquí

porque era muy difícil era muy difícil en un futuro

abordaremos un debate más serio y sosegado un debate que no se produjo hace un año en esta cámara pero aquí y ahora

egun on mahaiburua mahaikideak legebiltzarkideok gonbidatuak nos cuidan cuando nacemos en nuestra infancia
cuidamos a lo largo de la vida somos cuidadas cuando lo necesitamos pero especialmente

hoy empezamos el pleno con uno de los temas con mayúsculas que nos está dejando la pandemia uno de los más dolorosos y sangrantes lo que se ha vivido

no tiene nombre pero sí calificativo doloroso y sangrante

quiero dedicarles unos segundos a los cientos de personas que están en las residencias de nuestra comunidad viviendo resistiendo enfermas o perdiendo la vida

también quiero dedicarles un momento a sus familias que en muchos casos se han visto privadas de poder acompañarles

ligado a ellas las asociaciones y plataformas ciudadanas que están denunciando e impulsando iniciativas por un cambio en los modelos residenciales

de nuestra ecuación y a las que tenemos que escuchar pero hoy quiero mencionar especialmente en el inicio de esta intervención a las trabajadoras de las residencias beraiek ere prozesu horiek

ez baita eboluzionatu sus reivindicaciones han sido siempre de una lógica aplastante y una justicia social incuestionable o lo que es lo mismo demandan tan solo unas condiciones de trabajo dignas en el sector y unos cuidados de calidad para miles y miles de usuarias y usuarios de sus residencias

sus diputaciones solo han apostado por impulsar un ámbito de negocio con nuestras mayores en lugar de ser la institución que vigila impulsa y garantiza el derecho de ellas y de sus cuidadoras vemos instalada la precariedad la desigualdad y la brecha salarial en las trabajadoras del sector con unos ratios absolutamente escasos que traen consigo una calidad asistencial totalmente inadecuada ayer mismo las acompañamos y apoyábamos en su jornada de huelga bueno solo a unas pocas porque

que obligaba a mantener el cien por ciento de los servicios mínimos de enfermería

así como el noventa por ciento de lavandería y el cincuenta por ciento de cocina resulta incomprensible que un servicio que se declara esencial

en el ámbito de la protección de sus trabajadoras una incongruencia más de este gobierno

familiena eta langileena pero qué se ha hecho desde las instituciones zer egin dute instituzioetatik gobernutik

exponencialmente la terrible situación de contagios y muerte que se vivió

y emocionalmente y ahí todas fuimos conscientes de que eran esenciales

de las empresas y diputaciones forales que incluso siguen sin responder a la petición de negociación aldundien eta enpresen jarrera ez duina eta onartezina da

arrisku larria eta erreala da desde la asociación helduak adi comprometida con las personas mayores nos hacían llegar hace unos días su preocupación por la situación de las personas

que ha pasado a centrarse en las personas que más lo necesitan muchas de ellas personas de más de sesenta y cinco años

ha demostrado la vulnerabilidad de este importante segmento de la población

sobre la privatización y el lucro relacionado con las residencias a mejorar ratios a tocar las infraestructuras a no contar con las residencias

y a tenerlas más en cuenta que nunca a la hora de diseñar políticas que les competen y nosotras suscribimos estas reivindicaciones desde elkarrekin podemos izquierda unida venimos denunciando la inexplicable falta de liderazgo y de transparencia que gobierno vasco y demás instituciones vascas han tenido en un ámbito de su competencia

y que la grave situación de las residencias no es consecuencia de la crisis del coronavirus no esta crisis como la punta del iceberg ha puesto en evidencia y ha agravado la crisis estructural

ondorioa da y aquí vuelvo a recalcar la necesidad de repensar y crear el sistema público de cuidados

un sistema que sea fuerte público comunitario integral integrado que asegure la calidad de los mismos y sobre todo que esté centrado en las personas

oso pribatizatuta feminizatuta eta prekarizatuta dauden zerbitzuei si no nos hundiremos y hoy nuestra propuesta en este asunto

a las de euskal herria bildu quiero destacar como propias cinco la de la primera la de dotar

que garantice una atención personalizada a las residentes no solo para paliar la crisis vivida sino para la prevención

de la salud de nuestras mayores reducir la dependencia y promover su autonomía debemos huir del asistencialismo del modelo residencial y brindar una asistencia de calidad

jartzen ez duena atzean utziz el segundo reforzar con urgencia la cartera de servicios sociales del servicio de atención a domicilio con bolsas extraordinarias de empleo el tercero reforzar la inspección laboral asegurando que todas las trabajadoras en residencias dispongan de equipos de protección adecuados

intervenir en las infraestructuras es el cuarto en los espacios en las habitaciones hay que evitar que el aislamiento físico sea aislamiento social y aislamiento emocional

privadas de las que no se sabe con certeza su situación no se debería poder subcontratar a empresas privadas que no tengan convenio laboral el cuidado de los mayores y la salud de las trabajadoras debe ser garantizado baita ere

nos cuidan cuidamos somos cuidadas y así en este círculo se mueve cada una de nuestras vidas las vuestras las nuestras la mía sin covid pero especialmente con covid

qué tiene que pasar para que se ponga en el centro la vida nosotras siempre lo hemos tenido claro y seguiremos insistiendo por un sistema vasco de cuidados

focos de contagio en esta crisis de la pandemia y que

un número importante de fallecimientos podemos decir según los datos a los que hemos tenido acceso y los datos que se han hecho público que en esta segunda ola de la pandemia el treinta y seis por ciento del total de los fallecidos se ha producido en las residencias vascas lo que supone ciento tres personas creemos como empezaba mi intervención

y además en una sociedad en la que se ha caracterizado por estar en muchos momentos a la vanguardia de las políticas sociales cuya competencia principal

pero también el gobierno vasco tiene competencias de coordinación

creemos que es necesario en este momento realizar un análisis exhaustivo

pandemia los datos están ahí por lo tanto no se pueden negar

meses por parte del gobierno vasco y también

de las diputaciones pero sobre todo yo quiero y dado que estamos en el parlamento vasco pues hacer una referencia expresa a la gestión del gobierno vasco

por cambios en los protocolos que también ha contribuido a que las propias diputaciones forales se hallasen en algunos momentos un tanto

a qué pautas debían seguir también hemos visto que no se han

principalmente entre el personal sanitario el personal que trabaja en las residencias creemos que también eso fue un problema y que sin duda que si hubieran realizado todos esos test si hubiera habido los equipos de protección también suficientes

nosotros hemos puesto de manifiesto las deficiencias de múltiples debates y declaraciones públicas y en concreto uno que se produjo en la diputación permanente

sobre la gestión como decía de la crisis del coronavirus en el año dos mil ocho

en el año dos mil ocho se aprobó la ley de servicios sociales argi dago aprobazio hau oso garrantzitsua izan zela momentu hartan

instituzio bakoitzak zituen eskumenak aurrera eramateko más tarde se aprobó el decreto de cartera que regulaba exactamente

las prestaciones y servicios que se tenían que prestar por parte de cada una de las instituciones también tenemos que decir que esta ley encomendaba

y como denunció el partido popular en numerosas ocasiones este desarrollo reglamentario llegaba tarde llegaba tarde

configuraba como derecho subjetivo el acceso a determinados servicios y prestaciones en ese sentido ya en el año dos mil dieciséis si no me falla la memoria en este parlamento vasco se llega a un acuerdo amplio en el que instábamos al gobierno vasco

hay un decreto que ha llegado tarde y además creemos que no ha cumplido las expectativas generadas en el sector y en la sociedad vasca como fue el decreto de centros residenciales en las que ya en dos ocasiones específicas esta cámara

a que se remitiera se aprobara mejor dicho en el año dos mil diecinueve y en el año dos mil veinte como decía este decreto no cumplió las expectativas generadas y aparte como yo también tuve ocasión de señalar

decíamos que incluso no se habían seguido las pautas que se recomendaban por parte de órganos específicos que habían

el informe de la comisión jurídica asesora y del ces en este sentido se aprobó en el parlamento vasco un acuerdo específico para que se revisara este decreto

aspectos que se recogen o propuestas concretas que se recogen en relación a deberes del gobierno vasco

pero sí que es cierto que en otras tenemos algún matiz y en ese sentido bueno no nos vamos a oponer a la a la enmienda de transacción alcanzada por los grupos eh bildu y podemos

la nuestra para someterla a votación nosotros como decía creemos que es necesario volver a revisar el decreto

de las previsiones tal y como se aprobó creemos que también

elaboren planes específicos de inspección como se recoge en la propuesta original creemos que igual es más oportuno hablar a nuestro entender que el gobierno vasco ejerza la competencia de inspección que se recoge en la ley de servicios sociales y en relación a los protocolos sí que podemos coincidir en algunos

señalaban en la iniciativa original en relación a las medidas preventivas en los centros esenciales actuaciones en caso de contagio y medidas de protección

la enmienda y voy finalizando señora presidenta la enmienda del partido nacionalista vasco a pesar de los intentos de aproximación original

de la portavoz del partido nacionalista vasco pues hombre se nos queda muy corta

esperaba algo más de ambición por parte o este grupo esperaba más ambición por parte del gobierno vasco que señalar que se implementando en colaboración con las diputaciones forales

también tenemos que hablar del espacio socio sanitario y en la propuesta que el partido popular del partido popular que se debatirá en próximas fechas pues hablamos

el gasto sanitario que acarrean y que están asumiendo como es

un convenio en cuanto los recursos sanitarios que está abonando la diputación foral de álava que se impulse un modelo integral de atención socio sanitaria coordinado con la red primaria

que es poco ambiciosa que se queda corta y nos gustaría en ese sentido bueno pues cierta autocrítica por parte del gobierno vasco que creemos que en un tema

la covid diecinueve ha generado muchos efectos sanitarios sociales y económicos y especialmente ha golpeado con dureza a las residencias de personas mayores en nuestro país y en el resto del mundo

un número elevado de fallecimientos contamos con centros públicos privados concertados los cuidados se prestan a nivel individual en nuestros hogares

ambos tipos de cuidados son esenciales y absolutamente necesarios la pandemia ha puesto claramente de manifiesto un problema latente en el ámbito de los cuidados

abonan salarios bajos a sus trabajadores con poco personal y deficientes recursos buscando el máximo beneficio económico tenemos que profundizar qué significa una vida decente y digna que satisfaga nuestras necesidades básicas donde la noción de cuidados es fundamental

en casa a hacerse cargo de sus hijos de sus mayores de sus dependientes las veinticuatro horas del día durante meses

las que principalmente se han encargado de los cuidados en los domicilios compaginando todo eso con el cuando era necesario la convivencia obligatoria ha incrementado también la violencia machista las empleadas de hogar han sufrido también las consecuencias por lo que se tomaron medidas

se ha realizado una crítica al funcionamiento del sistema en su conjunto y ha puesto en valor los trabajos necesarios y los consumos necesarios en nuestra sociedad

que hay que evitar adoptar políticas de ajuste que afecten a los servicios sociales y a los colectivos más vulnerables debemos de seguir

los servicios públicos como garantía fundamental y estoy de acuerdo con usted señora gonzález en que es fundamental contar con un servicio público fuerte por eso dentro del acuerdo de gobierno hemos dado una gran importancia a este tema las personas

del nuevo gobierno vasco nuestro compromiso es consolidar y reforzar los servicios públicos de salud y educación y garantizar

que contribuyan al desarrollo humano de la sociedad vasca el país vasco ha sido una comunidad pionera en la puesta en marcha de políticas de inclusión

eso no lo podemos olvidar los avances producidos han sido importantes pero somos conscientes también de que abordamos en estos momentos un periodo crítico por eso en el acuerdo de gobierno manifestamos nuestro compromiso para avanzar en su eliminación y lograr una sociedad cada vez más justa equitativa y solidaria

vamos a garantizar y reforzar las políticas sociales en especial aquellas que inciden en el ámbito de inclusión social los servicios sociales y la vivienda y tiene un impacto significativo en la lucha contra la pobreza las personas mayores la familia y la infancia así como

se reconoce también en el acuerdo el compromiso de desarrollo del sistema vasco de servicios sociales atendiendo al enfoque comunitario y a los principios de calidad

y para ello se recoge que se procederá a elaborar el segundo plan estratégico de servicios sociales y consolidar el fondo

con el objeto de garantizar las prestaciones de servicios contemplados en el decreto de cartera de servicios sociales planteamos evaluar y culminar esta cartera de prestaciones del sistema vasco de servicios sociales en especial en relación a la atención

de cuidado prestación asistencial alojamiento y atención dentro del acuerdo de gobierno nos comprometimos también a adecuar el decreto

operativas consecuencia de la covid diecinueve se recogía que se impulsará una normativa que regule el régimen de concertación de servicios

de los mismos asimismo se recoge que se realizará un seguimiento de la inversión

potenciando los servicios a las personas que reciben en su domicilio habitual para garantizar su plena autonomía

si quieren seguir viviendo en su casa o quieren acudir a otros centros para ser atendidas

interinstitucional de lucha contra la soledad no deseada

y se reforzarán los programas de respiro a las personas cuidadoras y también que se impulsará un nuevo modelo integral

sociosanitaria coordinado con la red primaria de asistencia sanitaria para personas mayores y se hace referencia también a la estrategia vasca de apoyo

es decir en definitiva hay muchísimas medidas recogidas ya dentro del acuerdo de gobierno que pone encima de la mesa la importancia

se ha dado precisamente a lo que hoy estamos debatiendo es decir a la importancia que tienen los cuidados es importante realizar un planteamiento de cuidados a largo plazo empezando desde las personas mayores

prolongándolo también lo más posible si ellos quieren quedarse allí ofreciéndole las alternativas que necesarias para

y luego también en este proceso definir qué estrategia integral queremos a futuro eso también es importante por eso

enmienda a la totalidad la enmienda firmada por el grupo nacionalista vasco y socialistas vascos y

ya que es el segundo debate que tenemos sobre el ámbito de cuidados

la cantidad y la multitud de medidas que el propio acuerdo recoge sobre esta materia y la importancia que precisamente tanto para el partido socialista como partido nacionalista vasco le damos al ámbito y a la necesidad de hacer

integral en este ámbito y por eso hemos defendido esta enmienda porque muchas de las cosas que nosotros vamos a poner en marcha

es un compromiso firme para esta legislatura y no hace falta

absolutamente todas esas medidas dentro de nuestra enmienda transaccional

encima de la mesa también porque eso también está ahí aunque no esté recogido específicamente dentro de nuestra enmienda a la totalidad y nosotros ya debatimos en el anterior pleno y se aprobó ya que nos evidentemente que estábamos de acuerdo en la necesidad de modificar

de residencias también he dicho que ese compromiso es que ya anteriormente a que se aprobara

es que ya lo recogíamos porque lo veíamos necesario dentro del acuerdo de gobierno y además ponemos encima de la mesa los dos puntos que recoge nuestra enmienda

hace referencia a que se continúe implementando en colaboración con las diputaciones forales este plan de contingencia sociosanitario general

sociosanitaria coordinado con la red primaria de asistencia sanitaria y social para personas mayores que como ya he dicho

también dentro de nuestro acuerdo de gobierno no hemos podido llegar al acuerdo en la enmienda transaccional nosotros lo intentamos pero eso no quiere decir que necesariamente tengamos que ceder hay veces que podemos considerar que es mejor quedarnos con nuestra enmienda a la totalidad y en este caso es lo que hemos hecho nada más

irailaren zortzian bertan ignacio garitanok osakidetzako zaintza planaren koordinatzaileak zera zioen nos ha sorprendido la prontitud de esta segunda ola irailaren hamaseian garitanok zioen la segunda ola está

salud considera que el pico de la segunda ola se ha superado pero solicita prudencia

diría que el pico de la segunda ola se ha superado pero hay que remarcar que es mucho más prudente valorar con semanas de evolución que con días en este sentido prudencia y ver los datos

la estabilización de la segunda ola que lleva ya unos días siendo una evidencia en los datos de positivos parece confirmarse este miércoles en los datos de fallecimientos

en una pandemia la tendencia es la misma si ha pasado el pico de la segunda ola yo diría que si la tendencia se mantiene sí pero vamos a ser prudentes y observar los datos urriaren batean urriak batean la pandemia ha dejado en las últimas horas en euskadi trescientos ochenta y cinco nuevos casos de covid diecinueve en las

la menor tasa de esta segunda oleada de la pandemia urriaren lauan ordea portzentaia ehuneko

con las recomendaciones de la oms ehundaka izan dira azken aldian egoitzetan kutsaturiko pertsonak

un total de setecientos dieciséis usuarios de residencias vascas han fallecido por covid desde el inicio de la pandemia lo que supone el treinta y seis coma seis por ciento del total de muertos por coronavirus en euskadi hacia referencia la señora garrido cuál es el porcentaje en alemania o en austria en alemania estamos hablando de un treinta y siete por ciento

ellos lo valoran positivamente dadas las circunstancias aun así esto no es

de un treinta y seis por ciento son pérdidas humanas baina zerbait ondo egin dela den islada izan daiteke

centros que se convierten en ecosistemas perfectos para el contagio del virus porque conviven personas de alto riesgo por la edad donde muchas de las personas residentes no son autónomas

empezando desde que las personas mayores viven de manera autónoma en sus domicilios

posible esta autonomía mediante apoyos y ofrecer alternativas al domicilio acordes a los proyectos de vida deseos y necesidades de las personas mayores

cuáles han sido los puntos débiles de la atención socio sanitaria que los ha habido cómo se han reconducido las situaciones porque se han reconducido y en base a lo aprendido

siempre en colaboración con las instituciones competentes en prestar dichos servicios el gobierno vasco y el departamento están trabajando en esta cuestión

desde el comienzo de la crisis sanitaria del coronavirus en todo momento el departamento de salud ha estado ofreciendo orientación inspecciones recomendaciones protocolos indicaciones apoyo a los centros de personas mayores de toda euskadi desde entonces

y los ayuntamientos y esto da lugar a contacto permanente entre el gobierno diputaciones forales

residencial de personas mayores y personas con discapacidad de los servicios municipales de ayuda a domicilio la colaboración interinstitucional como decía

gracias señora presidenta buenos días señores y señoras parlamentarios en primer lugar

ahínco en las residencias de personas mayores tanto del país vasco como del resto de españa al margen de cualquier otra consideración mis condolencias y las de todo mi partido con quienes han sufrido las peores consecuencias de esta pandemia de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus lamentar también la reiterada inacción de las administraciones

gestores y trabajadores de residencias de mayores sin que se hayan tomado las medidas necesarias para evitar el tremendo impacto de covid entre sus residentes y familiares

una de cada tres residencias de españa no está preparada para afrontar nuevas olas de contagio llama la atención que el equipo de gobierno se conforme con retórica con una enmienda carente de la más elemental concreción gestión

sociosanitarios o modelo integral de atención socio sanitaria palabras con las que salir del paso pero que nada significan

y que ha llegado ya la hora de que quienes tienen la responsabilidad de hacerlo hagan realidad ya ese espacio sociosanitario de coordinación entre atención sanitaria y atención social un modelo del que ustedes vienen hablando hace ya muchos años pero que dista mucho de ser una realidad mención especial merece el papelón que el vicepresidente segundo del gobierno ha venido realizando en este ámbito de las residencias

o atacando de forma injustificada a las residencias privadas o concertadas centros residenciales en los que con muy escasos recursos

por la salud de residentes familiares y trabajadores no merecen ese trato y aun menos de quien ostenta un cargo de responsabilidad como el que ocupa el señor iglesias en definitiva estamos con las personas mayores creemos que ha llegado la hora de apostar por un modelo residencial de calidad

había preparado este debate con la mayor de las diligencias con el mayor de los celos he dedicado

había preparado un sinfín de datos que por ejemplo demostraban

ejemplos de otras administraciones como nafarroa que ya ha ubicado sus centros a día de hoy o cataluña que ha anunciado la contratación de casi dos mil

diferentes para ir desmontando poco a poco esa producción

que han abierto los grupos del gobierno pero voy a hacer algo poco habitual voy a hacer algo muy poco habitual renuncio rompe el papel de su discurso suele decir mi compañera que lo personal es político llevo quince años luchando en el ámbito de los servicios sociales trabajando en el ámbito de los servicios sociales y ya esta situación personalmente o sea solo siento

no quiero participar en esto no quiero participar no quiero convertir este debate

no cuenten conmigo no voy a participar es la cuarta ocasión que decidimos no actuar es la cuarta ocasión y eso es un fracaso colectivo colectivo no se lo estoy diciendo a usted es un fracaso colectivo de responsabilidad desigual pero fracaso colectivo así que me voy a limitar

a la exconsejera murga y a decirles que hay personas que en nuestros centros siguen enfermando sufriendo y falleciendo porque no adoptamos medidas

no soy capaz de transmitir eso pues lo siento eskerrik asko

nire solidaritatea anderrekin es difícil que se hable de

cuando vemos que ante temas tan importantes y tan trascendentes

marcan claramente los bloques y las diferencias el gobierno de coalición con la oposición y lo marcan aquí y lo marcan de cara a la ciudanía y auzolan es no solo hacer el trabajo

es que ese es el que corresponde ese es el que hay que hacer en las diputaciones el gobierno vasco los ayuntamientos las empresas subcontratadas es que ese es el trabajo que hay que hacer

y es el que tenemos que entendernos sabemos que el tema legislativo

estén esos planes estratégicos esas evaluaciones ese desarrollo de carteras

para alargarnos tiempo y tiempo

de consenso pero estamos en un momento que lo que estamos proponiendo hoy aquí son unas medidas muy concretas muy concretas

lo que no acabo de entender y a mí me pasa al contrario que a ander que lleva quince años y yo llevo prácticamente quince días aquí como ciudadana con unos ojos

no entendería lo que pasa porque si leemos seguramente en su acuerdo y leemos las medidas que nosotras traemos hoy aquí van en consonancia ahí lo dejo

tirar de estadística y hacer una comparativa en cuanto a las cifras yo creo que un solo fallecido en las residencias vascas hubiera merecido una reflexión por parte

del gobierno vasco el que haya muchas medidas en un acuerdo de gobierno

en el pleno de investidura el lehendakari anunció una serie de compromisos

y esta parlamentaria cuando estaba oyendo con absoluto respeto al que es el lehendakari se supone de todos los vascos

rememorando el pleno de hacía cuatro años señor lehendakari

hizo referencia a compromisos de leyes concretas leyes que fueron las mismas que usted anunció

por lo tanto creo que ya no valen excusas y digo esto porque

es lo suficientemente importante y relevante que debería acaparar bastante atención y dedicación por parte del lehendakari y por la parte

la verdad es que me sorprende que desde los grupos que apoyan al gobierno

que es intención del gobierno vasco revisar un decreto que lo conocimos hace un año es que las cosas entonces no se han hecho nada bien por parte del gobierno un decreto que tardó en llegar por lo tanto creo que también

convendría hacer algo de autocrítica yo espero que llegado este momento pues el gobierno vasco ya de un arreón de una vez por todas que es lo que está esperando la sociedad vasca que es lo que está esperando el sector

están esperando las familias y las personas mayores un sector claramente vulnerable de nuestra sociedad y como se ha demostrado

de esta pandemia y desde luego también que este gobierno vasco con el lehendakari a la cabeza haga una revisión autocrítica

de los aspectos y de la propia gestión que ha hecho de muchas cuestiones entre ellas de los centros residenciales

de una vez por todas también asuma las competencias que le corresponde en materia de coordinación y en materia de inspección como digo en un tema importante tan importante como es

mire señor lehendakari hoy nos hemos hemos conocido en los medios de comunicación que usted ahora

tengo que decirle mi decepción y que creo que ese anuncio llega tarde señor lehendakari creo que

una mayoría entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista esa mayoría

entre ustedes desde luego no puede servir de excusa para afrontar los retos que tenemos como sociedad y los retos que tiene el gobierno vasco

en esa ronda que como digo que se tenía que haber producido antes por deferencia a la pluralidad de la sociedad vasca a la que usted tantas veces hace referencia por deferencia también y por respeto a los momentos que estamos viviendo por respeto también a esa unidad y a esos acuerdos amplios a los que usted alude que no estamos viendo

de involucrarse más en las materias concretas como hoy las que estamos viendo sobre los centros residenciales

de contactos realmente se aborden cuestiones prioritarias para la sociedad vasca y desde luego uno de esos temas

los sectores que lo están pasando mal desde luego sea la situación de nuestros mayores

adquirió la pasada legislatura y que no ha cumplido sea el envejecimiento de la población sea la situación de las residencias y de una vez por todas

a ver señora garrido reflexión se está haciendo

cuando se aprobó el decreto de residencias en el dos mil diecinueve nadie podía imaginar que podíamos sufrir los efectos de una pandemia como la que hemos vivido obviamente si no se hubiera realizado seguramente

hemos indicado dentro de nuestra enmienda a la totalidad la necesidad de hacer esa revisión de ese modelo integral nos hemos encontrado con una realidad

producir cuando empezó la pandemia empezaron los confinamientos cerramos nuestras residencias no sabíamos qué tiempo iba a durar siquiera

al principio también se pone ahora encima de la mesa que hay que valorar el equilibrio entre la protección a la salud de todas las personas mayores dentro de las residencias con

la influencia que puede tener esos confinamientos tan alargados sobre su salud mental al privarles de tener ese contacto continuo con sus familiares que es muy importante también para ellos pero que se hizo

en proteger a su salud tenemos que evaluar todo y corregir nuestro sistema vasco de servicios sociales y adaptarlos desde luego a esta realidad ya he puesto encima de la mesa que dentro de nuestro

un montón de medidas y señora gonzález yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho usted es que en muchas de las cuestiones estamos de acuerdo es que yo ya he puesto encima en mi primera intervención encima de la mesa

preocupaciones que nosotros tenemos y un montón de medidas que se recogen dentro del acuerdo que además en algunas algunas de ellas coinciden

estamos de acuerdo pero claro si no estamos de acuerdo con la totalidad de la enmienda transaccional y con puntos que se recogen dentro de la misma pues al final no llegamos al acuerdo de

y consideramos que es mejor defender la nuestra y eso es lo que hemos hecho eso es lo que hemos hecho hay puntos como en la enmienda original se recogía por parte del señor

que se inste al parlamento a recuperar las competencias que las administraciones vascas ostentaron durante el estado de alarma vamos a ver lo que se recogió

y vienen jurídicamente y se posibilita el estado de alarma poderlas recibir no se pueden pedir ahora que se tengan

pues tienes otras posibilidades por ejemplo por poner un ejemplo por eso nosotros vamos a defender nuestra enmienda a la totalidad

ustedes que el problema es que se utilicen escasos recursos yo también estoy de acuerdo con eso

entre el ámbito público de los servicios públicos y el ámbito de residencias privadas pero el problema es que se ha visto que esta pandemia ha puesto también encima

no invierten ni aplican los recursos suficientes es verdad estoy de acuerdo que a veces el problema ha sido que

hay que corregirlo porque eso evidentemente la pandemia ha puesto ese problema encima de la mesa de una forma

como un negocio empresarial pero

todo el modelo hay que ver todo lo que se ha puesto encima de la mesa y nosotros desde luego estamos dispuestos
a ello y es un compromiso del gobierno vasco nada más eskerrik asko sánchez andrea

colectiva también hablaba de que la responsabilidad es desigual yo no lo creo euskal herria bilduk egindako erdibideko proposamen

cuál es su modelo y qué es lo que quieren hacer tendrían que comentarlo guk eredu ezberdinak defendatzen ditugu eta hainbatetan esan dugu

nuestro modelo es el de la ley un modelo descentralizado y participativo compatible con normas universales la ley de cartera decreto de servicios instrumentos comunes de valoración diagnóstico orientación

y que introducen equidad en la asignación de recursos una gestión integral y colegiada que permitirá seguir avanzando en universalidad

adoptando los apoyos a las necesidades este es el compromiso de este gobierno vasco continuar fortaleciendo y mejorando un sistema clave para asegurar la igualdad de oportunidades la igualdad de mujeres y hombres y la cohesión social y en eso me parece que estamos todas y todos de acuerdo

y es que una de las características esenciales de las regiones monoteístas

de la veracidad universal y absoluta de sus dogmas estas verdades las verdades religiosas son revelaciones que se contiene en los libros sagrados libros escritos por sus profetas e interpretados por los sabios los teólogos de cada comunidad religiosa

ni su legitimidad se sitúan en el pensamiento racional propio de las decisiones jurídicas y desde luego tampoco como resultado de la voluntad de la ciudadanía democráticamente expresada en la lucha por esa hegemonía normativa

en tanto que aparato de poder político y representante del pueblo soberano logró imponerse como sujeto titular del monopolio de las normas de carácter jurídico ya emancipadas de esa verdad religiosa y en este contexto y para que la razón democrática sea la única que guíe la actuación del estado

la laicidad lo que prescribe entre otras cosas es la neutralidad del estado la separación del estado con respecto de las organizaciones religiosas y en qué se concreta

en si pensamos en términos de libertad religiosa y si vamos atendemos a los estándares

aceptados en todos los contextos de todos los estados democráticos como derecho de carácter digo en tanto que libertad religiosa

implica un derecho en dos dimensiones

precisamente ligada al modo en el que las instituciones manifiestan ejercen la neutralidad es decir la neutralidad del poder público la neutralidad del estado la neutralidad del poder político

religiosa de la ciudadanía si se admite el pluralismo religioso en términos democráticos también es comúnmente admitido es un estándar también comúnmente admitido que el estado no puede imponer a sus ciudadanos prácticas que estén ligadas a una religión determinada es un fundamento básico mínimo

insoslayable pero ni siquiera puede tampoco el estado y esto también está comúnmente aceptado

emitir apreciación alguna sobre la legitimación de las creencias religiosas o sobre la manera en que estas se expresan la separación

identificarse ideológicamente con ninguna confesión

esto implica que uno y voy a pronunciar palabras que vienen en la jurisprudencia tanto constitucional

de los tribunales europeos de derechos los valores los intereses religiosos no pueden erigirse en parámetros para medir la justicia de las normas y actos

dos no puede haber confusión entre funciones estatales y funciones religiosas

el estado no puede proteger a unas religiones en detrimento de otras ni puede caber discriminación de los ciudadanos en función de su ideología o creencia religiosa resumiendo todo estado constitucional

que se defina en base a elementos de separación neutralidad y la defensa del principio de igualdad en el disfrute

es un estado es un poder político es un sistema de gobierno laico y en estos estados en estos sistemas de gobierno

se libera al estado de la religión a la vez que queda obligado a separarse

pueden darse relaciones de colaboración en función de los intereses legítimos de la ciudadanía y como servicio público a la ciudadanía pero como poder político el poder político y la religión están separados por parte de la ciudadanía no de los poderes públicos la ciudadanía sí es libre de elegir la creencia religiosa que considere oportuna

con sus dogmas al tiempo que está obligada también a respetar la libertad

la neutralidad del estado laico exige que ninguna opción particular sea religiosa

de las ideas trascendentales del ser humano la neutralidad del estado laico exige que ninguna opción sea religiosa

ni positiva ni negativamente no caben

de una opción cualquiera que sea esta en un estado en un sistema de gobierno que se define como laico es que solo así se garantiza la igual consideración de todos los individuos como ciudadanos libres

la defensa del pluralismo ideológico en pie de igualdad como regla fundamental de un estado de derecho y también el establecimiento de un marco jurídico

interferencia de instituciones religiosas que implique ventajas o privilegios pues bien dicho todo esto

cuando los representantes públicos participan en tanto que representantes públicos en actos religiosos

como parte del contexto de sus acciones referencias religiosas

que los miembros del gobierno en el ejercicio de su cargo muestren vínculo alguno con una determinada confesión religiosa hasteko argi utzi nahi dut

ezinbestekoak dira y en esos términos precisamente se enmarca el primer punto de nuestra enmienda a día de hoy hay muchas cuestiones que nos preocupan y nos ocupan con respecto a las políticas que guían a este gobierno de coalición pero siento decirle que el último lugar de la lista lo ocupa el vínculo religioso que tenga el señor urkullu o el resto de miembros del gobierno

su cargo humillado ante dios sobre el viejo fuero de bizkaia o sobre el corán si fuera el caso

lo que realmente importa y nos importa es

para qué contando con quién y mirando a quién ha habido muchas fórmulas se ha utilizado la fórmula del lehendakari jose antonio agirre el señor patxi lópez utilizó otra y en un futuro

otras los consejeros y consejeras también tomaron su cargo de diferente manera algunos en euskera otro en erdera y otros en los dos idiomas pero pues no creemos que sea el caso

sería si esa vinculación religiosa realmente afectase a nuestro entender de manera negativa en el tipo de políticas que llevasen a cabo y ahí sí que ejerceríamos nuestra labor de control al gobierno

solamente el hecho de tomar su cargo de esa manera pues creemos que no tiene influencia y por otra parte creo que además debemos de tener en cuenta como he dicho hace un momento que hay que velar por las diferentes sensibilidades de la ciudadanía siempre

y ese es el espíritu de nuestra enmienda que a nuestro entender va mucho más allá que la propuesta original y para lograr todos esos objetivos que acabo de enumerar

sosegado y mucho más profundo que el que se nos propone que no quiero decir

pero creemos que tiene que ir mucho más allá de una proposición no de ley por lo que supone

aunque creemos que el sentido con el que se ha traído a colación es profundamente desafortunado

demostrando una falta de finura evidente en el ejercicio de la interpretación de la historia efectivamente

la aparición del estado laico y francamente no es así dicen bien cuando dicen que el laicismo se dice de muchas maneras

primero hablan de la separación entre estado e iglesia ocurre lo mismo en los países de oriente medio que financian su partido segundo neutralidad

no sé ustedes pero este debate ya está recogido en la constitución y ampliamente desarrollado un caso obvio es la colaboración con el concierto entre gobierno y colegios religiosos una tarea que la iglesia católica lleva siglos realizando y que podemos calificar como beneficiosa

y su defensa de la labor social de la iglesia en cualquier caso

que dice textualmente nadie debe ser incomodado por sus opiniones inclusive religiosas siempre y cuando su manifestación no perturbe el orden establecido por la ley tercero igualdad en el ejercicio de la religión de la libertad religiosa he de recordarles que nuestra constitución

recoge con claridad este principio los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral

vuelven a hacer gala de su condición de izquierda divagante con una preocupación completamente alejada de la realidad de nuestro tiempo en cualquier caso a pesar de lo indefinido de su propuesta hemos deducido una defensa del aconfesionalismo

el estado es un ente absolutamente independiente de la iglesia de este modo sería plausible eliminar cualquier atisbo de religiosidad porque a fin de cuentas estado e iglesia están completamente separados una teoría materialista del estado

en la práctica se trata de una realidad indisociable porque en muchos casos ambos planos están entremezclados iglesia y estado tienen planes y programas que intersectan entre sí

en vox creemos que el ejercicio de la política debe estar fundamentado en la prudencia y el buen gobierno y respecto a estas cuestiones en un aconfesionalismo diferencial a saber que el estado

según referencias del gobierno vasco un ochenta por ciento de la población es católica sería prudente que el estado diese la espalda a tal número de creyentes podemos renegar de esta realidad

cuál es el riesgo que ustedes han detectado para la sociedad española en la presencia de confesiones religiosas en los distintos actos públicos muchas gracias

buenos días presidenta gracias lehendakari consejero consejera señorías bien

qué decir y precisamente el otro día cuando llegaba al parlamento pasaba por ahí por los paneles por la exposición fotográfica que había fuera la celebración

del cuarenta aniversario y dije ahí falta uno falta un panel cada panel tiene cuatro o cinco fotografías y faltaba uno entonces me acordaba de cuál era faltaba el panel de la visita del dalai lama

parlamentarias que estábamos en aquel momento y faltaba el panel

y se han llevado el panel porque claro esto de los actos religiosos ligados a las instituciones públicas ya han venido los de podemos y se han llevado el panel llamé a protocolo

que por el viento o que alguien lo había tirado bueno en cualquier caso parece que su señoría

donde salía el dalai lama en cualquier caso señora gorrotxategi estamos ante una

política que es un ejemplo de declaración improductiva esta y la siguiente proposición no de ley para este pleno desde luego son ciertamente improductivos lamentablemente no es un debate sobre laicidad es una pretensión de restringir

a la realidad de la sociedad también alteradora de nuestras tradiciones más arraigadas y sobre todo llena

animadversiones convierten además al laicismo

tampoco es bueno esta pnl no aporta nada

y no expresa más que concepciones agrias demoledoras de conciencias de libertades de pensamiento y uniformizadoras

podían haber hecho una pregunta una interpelación al lehendakari en relación

hecho es que nos lancemos o ustedes sobre todo a una piscina vacía de sentido no tiene ustedes además lo mezclan todo

es igual de civil que lo medioambiental lo sindical lo musical o lo gastronómico es igual de civil lo religioso también y lo eclesiástico por qué no cada uno de nosotros lo graduamos

pero es igual de civil o de ciudadano el obispo los sacerdotes son igual de ciudadanos que usted o yo que el lehendakari que los letrados que nos acompañan que el resto de los ciudadanos son iguales igual de ciudadanos y tienen su espacio en la sociedad pues como todos los demás

que en su punto dos que no serán invitados a actos civiles representantes religiosos es que no tiene sentido eso y además vaya contrariedad no o sea no podemos y no puede invitar

en sus actos actos de cooperación actos de derechos humanos a tantas personas que desde su pertenencia

órdenes religiosas o a movimientos religiosos o a una universidad

una asociación religiosa de acogida a inmigrantes o personas desamparadas un grupo de monjas

religiosos cuidadores de ancianos y personas en situación de pobreza que colaboran con las instituciones públicas es decir a misioneros vascos que levantan escuelas y hospitales en países del tercer mundo no pueden ser invitados a actos civiles no puedo dar crédito a que usted piense eso es decir o sea no tiene ningún sentido señora gorrotxategi vamos a ver no podemos entregar no pueden entregar el premio

de la agencia vasca de cooperación del gobierno vasco porque

un teólogo jesuita rector de una universidad católica asesinado por la dictadura salvadoreña no puede no tiene sentido esa cabida de esa connotación religiosa dentro de lo que es una actuación de un departamento de un gobierno

más ejemplos hemos traído con la anuencia de su grupo en la mesa anterior el arco del convento de santo domingo y lo hemos puesto en la salida del parlamento fuera

lo contemplen los paseantes que pasan por la florida hemos hecho con su anuencia con la anuencia y es normal es un arco que fue de un convento que estuvo aquí y

en la entrada ya en la entrada interior tenemos a tobías

de los evangelios tobías y el ángel obra del maestro oteiza que este parlamento en su momento compró al artista juntamente con una obra de chillida

y pusimos entre todos los grupos parlamentarios a la sala tomás moro ese nombre entre todos los grupos parlamentarios

estaba la señora celaá estaba y todos firmamos estaba el señor larreina

cedimos a la mesa es el único nombre de este parlamento es la única sala que tiene un nombre propio

y por eso lo pusimos de los gobernantes y de los parlamentarios

con nuestras tradiciones con nuestras referencias con nuestra libertad

esta cámara invitó todos los grupos parlamentarios lo asumieron

emocionante singular en la que algunos de nosotros estuvimos presentes algunos de los parlamentarios yo supongo que sí el señor urkullu entonces era parlamentario el señor iturgaiz también estaba es decir algunos y algunos otros también

ciudadanos chinos protestaron pero bueno pero no pero sin más

tomando su agua templada nos dio con su manzana dentro de una copa con

el pañuelo blanco pues hablando de lo que él creía de lo que él pensaba

nos hicimos fotografías todos y él estuvo también muy agradable

cómo proceder en su con sus convicciones cómo proceder en su juramento

en este parlamento el representante de ezker batua se congratulaba

el día de san francisco javier se hubiese acordado como día de la comunidad foral interpretando el sentir de aquella sociedad

hay que respetar el sentir de las personas y se congratulaba y decía el día de san francisco javier como día

lo institucional con lo religioso también y con la tradición

esta cuestión a propósito de la fiesta de la comunidad autónoma vasca del veinticinco de octubre bueno

que esa fecha unía a todos pues aquí hay muchas cosas que nos unen a todos alguien ha recordado que el ochenta por ciento

con lo católico de una u otra manera pues ese es el elemento fundamental

en posición dura ahora supongo que esta iniciativa bueno dentro de

los grupos parlamentarios los partidos políticos servirá para otras iniciativas a otro nivel

en los municipios de euskadi que se deje de celebrar por poco civil

el día de san prudencio o el día de san sebastián o la virgen de begoña o el día de reyes o la semana santa o la virgen en tantos puertos pesqueros de nuestra tierra es decir

si hubiese un lehendakari que jurase sobre la hoz y el martillo ustedes seguro que tan contentos pero

y sobre lo que él considera que tiene que jurar porque eso le da fuerza además para gobernar

y en el punto tercero quieren imponer esos no dejar

sea referencia de esos compromisos tan esenciales quieren

y en la conciencia de las personas además mire el propio gobierno vasco ha promovido a través

legislatura y que ahora presentará suponemos que lo traerá a esta cámara la creación de un consejo interreligioso

se quiere colaborar con las religiones con las diferentes religiones que están aquí se implantan aquí en las que creen

que viven aquí y eso es normalidad además que es bueno que tengamos
esa relación amaitu mesedez sí acabo

hay relaciones de estado o relaciones de los gobiernos

con todas ellas y eso es lo que debe de ser con absoluta normalidad no se puede estrechar el margen de la libertad de las personas con iniciativas

lo que pretende es censurar la forma en la que el lehendakari

política filosófica que además lo ha explicado ampliamente

pero con una total ausencia de fundamentos jurídicos en lo que se refiere al acto en sí que se pretende censurar y empezaré por esto último

es conocedora del reglamento de esta cámara y el artículo ciento sesenta y siete del reglamento establece cómo ha de celebrarse este acto y dice que es en sesión extraordinaria lo que se hizo dónde

allí estuvimos y con qué procedimiento que es juramento o promesa

de esta manera lo que cabe preguntarle es qué se ha hecho mal qué se ha dejado de hacer qué es lo que no se ajusta al reglamento cabe preguntarle de lo que se hizo en qué afecta a su actividad parlamentaria cabe preguntarle

o a su filosofía política cabe preguntarle si sabe o no que el procedimiento para modificar el reglamento no es el de la proposición no de ley

necesario modificar en este aspecto ciertamente el juramento puede tener una connotación religiosa no es necesario que la tenga pero puede tener

y en esta ocasión como pudimos apreciarlo la tuvo personalmente soy partidario de la promesa es una fórmula más íntima más personal no pone a nadie por testigo y no toca ninguna religión convirtiéndose

agnósticos y apóstatas pero me sorprende que

que usted también es partidaria de esta fórmula que en realidad persigue la idea del juramento haya mantenido en su proposición de ley la figura del juramento

no entiendo esta y otras contradicciones de su iniciativa salvo que la misma haya sido fruto de un calentón sin reflexión

ideológica religiosa y de culto de los individuos

a expresar y difundir libremente los pensamientos ideas y opiniones

invoca a dios no creo en él y mucho menos desde que tuve conocimiento de un refrán castellano que dice que dios no cumple antojos ni endereza jorobados pero sí puedo asegurarle que en esta cámara y de manera muy transversal entre sus señorías escuchar expresiones

o gracias a dios las encontrará en sus actas como digo de forma muy transversal

vayamos a la filosofía en qué afecta la expresión del lehendakari

a los derechos o a las libertades de todas las personas qué adoctrinamiento se puede desprender de esta forma de juramento para los presentes en el acto referido las instituciones vascas tras este juramento siguen siendo

igual de independientes respecto a cualquier organización o confesión religiosa la fórmula elegida por el lehendakari

al desarrollo político social cultural o económico de la ciudadanía o de sus instituciones

señora gorrotxategi el juramento ha pedido interpretándose

como un acto público y solemne con el objeto de asegurar el cumplimiento de los deberes políticos

por la diosa isis por el dios osiris por el toro sagrado apis

sin olvidar juramentos por el sol el aire el hierro el ajo

el juramento también se ha usado para confirmar un contrato para negar un delito o para justificar un derecho por eso en la época en la que vivimos

el control político del parlamento la acción de la justicia cuando proceda o la fiscalización del tribunal de cuentas

que el juramento o promesa por todo ello rechazaremos su propuesta eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak atutxa jauna zurea da hitza

que plantea el grupo elkarrekin podemos ezker anitza en su proposición no de ley que en gran parte van más allá de la fórmula empleada

podríamos decir que buena parte de ellas gira en torno a lo que se denomina gestión

también creemos oportuno recordar el informe sobre gestión positiva de la diversidad religiosa en el país vasco de diciembre de dos mil quince elaborado a petición de la secretaría general para la paz y convivencia en este informe

y recomendaciones específicas a seguir por parte del gobierno vasco en orden a lograr precisamente esa gestión positiva de la diversidad religiosa

y fruto de las recomendaciones contenidas también por el proyecto de ley de lugares centros de culto de la comunidad autónoma del país vasco

durante la legislatura pasada pero que tal y como se recoge en el acuerdo de gobierno entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi

como ven hay un compromiso de los partidos que sustentamos a este gobierno por avanzar en esta materia y hay un compromiso de este gobierno no solo palabras sino también por ir avanzando en este ámbito de convivencia apostamos por esa gestión positiva de la diversidad religiosa y no religiosa pero

no es en nuestra opinión gestión positiva sino impositiva por este motivo no compartimos buena parte de las cuestiones planteadas

que es necesario generar espacios de relación de relación estable normalizada y no precisamente espacios de exclusión en este sentido

concretamente el referido a la creación del consejo interreligioso vasco que el señor barrio ha recordado en cuanto a la fórmula empleada por el lehendakari

es que no pensamos que sea una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía vasca en este momento lehendakariak eusko legebiltzarreko mahaia ondoan duela

nosotros estimamos que el parlamentario o la parlamentaria

debe de tener la opción de poder establecer su propia fórmula de juramento dejando claro eso sí que se ha jurado de forma inequívoca así ha sido hasta ahora y así entendemos desde el partido nacionalista vasco que debe de seguir siendo

para elegir su fórmula tal y como hicieron sus compañeros y compañeras señora gorrotxategi

libremente pudieron elegir la fórmula para jurar o acatar la constitución del reino de españa como usted

seguramente hubiese elegido le hubiese gustado poder elegir la fórmula que usted deseara

el caso es que ha habido unas elecciones hay una mayoría y

pero en cualquier caso defendemos la posibilidad de que incluso dentro de cuatro años si así lo decide la ciudadanía vasca tenga la confianza de esta cámara

la fórmula que desee en cuanto a la enmienda del grupo euskal herria bildu consideramos que hay puntos hay un punto concretamente con el que estamos de acuerdo y hay cuestiones con las que bueno nos surgen dudas

en cuanto al proyecto de ley ya le he comentado que está dentro

volverá a esta cámara en el caso del punto segundo de esa elaboración de un inventario

necesidad es evidente y eso es así que hay espacios de culto en edificios públicos

asistencial e incluso penitenciario aunque este ámbito no es todavía de competencia de esta cámara y de este gobierno y está claro que en muchos casos deberá de avanzarse hacia la generación de espacios multiconfesionales o de otro tipo pero no vemos la necesidad de un inventario

y en el caso del primer punto de su enmienda pues las dudas que tenemos

bueno un desarrollo legal del tipo que ustedes proponen podría entrar en conflicto con

podría entrar en conflicto también con la ley orgánica de libertad religiosa y con esas distintas bueno sentencias del tribunal constitucional en la que han ido bueno pues haciendo esa reserva material

por lo tanto vemos que no sabemos hasta qué punto podríamos tener hueco si me permiten la expresión

en ese ámbito legislativo y por todo esto pues no vamos a apoyar

contiene puntos con los que estamos de acuerdo y puntos pues que tendrán que tener un desarrollo posterior eskerrik asko

el representante socialista me hablaba de ausencia de fundamentos jurídicos y de si tal vez fuera necesario la reforma del artículo ciento sesenta y siete

de abordar esta reforma normativa no la verdad es que no hay necesidad de reformar el reglamento es que el reglamento

que haya que jurar en nombre de dios por lo tanto no hace ninguna falta modificar el reglamento en todo caso me quedo con una

expresamente la connotación religiosa de la fórmula del juramento

ha habido una connotación religiosa en la fórmula

y que se inmiscuye además en la conciencia de las personas nada más

de la realidad precisamente el respeto

que los representantes públicos sean absolutamente y exquisitamente neutrales porque precisamente una de las patas indispensables de la libertad religiosa es la neutralidad de los poderes públicos

para la ciudadanía cuanto menos neutral es un poder político entonces el espacio

pues también en esta materia se produce la tradición la apelación a la tradición y al patrimonio cultural claro todos somos conscientes que nuestras festividades vienen

nadie y no nos vamos a poner a pelear contra ello porque tampoco tiene

pero cuidado cuidado con apelar de manera acrítica a la tradición para justificar cualquier

para impedir cualquier cambio porque nos podemos quedar

en cualquier sitio dice que no hay privilegios en esta manera en la fórmula elegida bueno yo creo que sí hay privilegio en el momento

a un cargo público con una determinada religión sí se está privilegiando una religión concreta cuando se produce esa identificación en todo caso me gustaría utilizar ya mis últimos segundos para hacer referencia a lo que comentaba la representante de bildu

me ha sorprendido poderosamente una cuestión y es que me dice ez da lehentasunezkoa

porque no es un asunto de comer es

esté diciendo que no es prioritario un tema porque no tiene que ver con los asuntos de comer eta gainera gero esaten du

yo voy a recoger la iniciativa original

que dice fórmula para la toma de posesión del lehendakari en la casa de juntas

y creo que esta desviación del debate ha sido absolutamente intencionada porque seguramente la pnl se ha quedado fuera de tiempo ya no corresponde

llevar el debate adonde interesaba a pesar de que en algún momento bueno algunos portavoces han vuelto otra vez al carril inicial

askatasunen buruzko araudia dentro de nuestras competencias porque el señor atutxa también se preguntaba dónde podría tener hueco dónde podríamos trabajar no bueno le voy a poner un ejemplo porque han hablado del anteproyecto de ley de culto que en la legislatura pasada se terminó sin poder

proyecto de ley había unos informes perceptivos que precisamente hablaban en este sentido esa podría ser una vía bizikidetza eta giza eskubideen plana

los parlamentarios y parlamentarias que me conocen en esta cámara saben que no me gusta

conmigo por lo menos no me gusta salir a esta tribuna a contar lo que en los pasillos o en los correos electrónicos se hace y no lo voy a hacer

pero alguna lección de cortesía parlamentaria sí que le puedo dar y ahí me voy a quedar y podía decir muchas cosas más y eso de que

solamente presentamos cosas de comer es un apellido que lo ha puesto usted y yo en ningún momento he dicho como el señor barrio también ha hecho mención a esa ley de culto el señor atutxa también ya sabemos que está en el programa del gobierno pero bueno aprovecho la ocasión
anunciarles que si en algún momento solicitan ustedes la votación por puntos no tendremos ningún problema en aceptarlo besterik ez eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea

voy a ser muy breve desde vox lo que creemos es que la propuesta de la señora gorrotxategi respecto a la jura del lehendakari no es otra cosa que

por otro lado le quiero recordar los improperios de la concejal de madrid rita maestre durante su asalto a una capilla

a la señora gorrotxategi como le he tratado de exponer en mi intervención

llenos rodeados de connotaciones religiosas que impregnan toda nuestra vida civil con normalidad y estamos rodeados y yo creo que eso hay que asumirlo no puede decir que lo religioso sea incompatible con lo no no puede serlo no lo puede decir porque lo neutral políticamente es una cosa

perfectamente el factor religioso y las convicciones el sentir de las personas

hay religiones que en el colmo de la neutralidad promueven el amor

y a todas las mujeres a todos no a los de mi barrio no a los de

más neutralidad que esa es difícil de ver y una tercera cuestión que es muy importante que es más importante de lo que parece sobre todo

es fundamental para la convivencia la tradición es fundamental para la convivencia como lo es la ley y sobre todo en sociedades como la nuestra muchas gracias

por mucho que nos empeñemos señora gorrotxategi las tradiciones las creencias

es una de las pocas cuestiones en las que el boletín oficial tiene una capacidad de cambio muy limitada nosotros estamos convencidos y convencidas de que este gobierno va a seguir trabajando por una gestión positiva de la diversidad religiosa en nuestra comunidad autónoma y que lo va a hacer

proteger los derechos de todos y de todas de creyentes y de no creyentes ese es el camino en nuestra opinión para generar convivencia también en este ámbito en nuestra sociedad es un reto y es un reto que tiene evidentemente muchas aristas muchas

suficiente operar con esquemas excluyentes o incluso con nuestras propias tradiciones ideológicas que no lo olvidemos responden a una realidad del siglo veinte y ahora lo que tenemos que estar trabajando y haciendo frente es a una convivencia en el siglo veintiuno eskerrik asko

nos jugamos demasiado no voy a repetir el diagnóstico y la situación que ha explicado rebeka

pero creo que de todos es conocido la situación de fuerte estrés y saturación y palabras también del portavoz del gobierno de tensión sanitaria que está viviendo

no es culpa de este gobierno ni mucho menos pero la no idílica situación del sistema sanitario sí que alguna responsabilidad parece que tiene la semana pasada estuvimos

y nos explicaban cosas mucho más allá de la pandemia de ese deterioro de las relaciones laborales y de la situación en osakidetza de una precarización y una sobrecarga

y esta situación se ha visto agravada como no podía ser de otra manera y por desgracia por el coronavirus una situación que afecta

de salud y luego otro tema que nos repiten no solo en sanidad pero también que es

la falta de diálogo con el departamento en los últimos

y la gran manifestación que vimos hace unos días creo que es fiel reflejo de esa afirmación que hacían hay algunas de estas situaciones como esta última la del diálogo que creo que son fáciles de comenzar

consejera esperamos que se ponga activamente con ello

el éxito de esta sociedad contra el virus y reconocemos y lo volvemos a decir que hay unas dificultades en la gestión de este tema y de cualquier situación

de este virus pero hay medidas que a pesar de que reconozcamos que la gestión sea difícil que están

faltan recursos y faltan dotaciones de medios humanos y creo que el gobierno tiene que corregir inmediatamente estos temas

semanas el trabajo realizado por los técnicos y técnicas de laboratorio es fundamental en ese sentido y a pesar del numeroso número de pruebas

laborategietan aritzen diren langileak y lo mismo pasa además con

fundamental para el control y la expansión del virus y no lo décimos desde elkarrekin podemos izquierda unida sino que lo dice el propio colegio de médicos que advierte de la necesidad de más

en nuestro territorio y lo volvemos a decir a mí no me interesa que me escuchen a mí y que escuchen al grupo parlamentario que represento pero sí que

hablando muchísimo mejor de lo que lo puedo saber yo y de lo que lo puede saber mi grupo y en ese sentido el primer punto va en la misma

una situación o una propuesta que les oímos teorizar y les oímos predicar mucho al gobierno vasco no solo en esta legislatura que es la de trabajar en equipo

a una pero es que el primer punto que la señora rebeka ubera les propuso en la transacción

cámbienle por comisión cambien esa palabra por cualquier otro sinónimo lo único que estaba proponiendo por tanto yo creo que

rechazo es trabajar en común los departamentos del gobierno diferentes entidades de investigación conocimiento e innovación de euskadi para fortalecer osakidetza

no sé qué pueden tener en contra del trabajo en equipo puede ser que tengan algún problema más con trabajar con profesionales que les dicen o que se atreven

críticas con propuestas que son todas las que hemos vivido en este país que tienen una suerte de gobernar euskadi porque la oposición y sobre todo los grupos que están trabajando

etcétera se están manifestando están criticando y están proponiendo y trabajando veinticuatro horas

de transmisión creo que evidentemente deberíamos de estar de acuerdo en esto y de extender las pruebas pcr y afortunadamente ahora que vamos a tener los test de antígenos estos

ayer vimos las imágenes de dos puntos ha hecho también rebeka ubera referencia a ellos dos puntos de cribados

esta iniciativa lo que estaba diciendo yo creo que todos nos vamos a felicitar

de bueno pues de una medida como la de ayer pero esta iniciativa hablaba de planificar

previsto ningún screening más

y esta iniciativa que además sin ni siquiera cuantificarlos lo que les estaba diciendo al gobierno a la señora sagardui es de planificar este

y ojalá fuera así más allá de lo que es el propio gobierno y planificarlo con las entidades de investigación y con todos los profesionales que participan en dicho proceso estamos hablando de ampliarlos y de planificarlos y ahí yo creo

si se presenta una planificación efectiva pues evidentemente la respaldaríamos y lo mismo y aquí

en una de las enmiendas de adición que habíamos hecho y que está por parte de nuestro grupo que está

en la transacción que es ampliar el personal de rastreadores

de muestra es verdad que ahora mismo cuando lleguen los test de antígenos seguramente se van a acortar los tiempos necesarios para

tener más personal en este caso más rastreadores porque es fundamental llegar adonde ahora mismo no se está llegando porque en el plan bizi berri

sistemático y periódico de las trabajadoras de mayor riesgo pero es que no se está haciendo de forma generalizada se está haciendo de forma

aleatoria y ahí están las demandas y las quejas de trabajadores y de trabajadoras especialmente de la sanidad y de la educación tanto en la esfera pública como en la esfera privada y

es una pena que este parlamento vuelva a no ponerse de acuerdo por que el gobierno ni siquiera en objetivos no cuantificables sino en un tema

desde este parlamento le íbamos a poner deberes al gobierno en torno a que planifique organice y aumente personal y que lo acuerde con los y las que están

ustedes capacitados para hacer ese acuerdo no sé qué colaboración van a poder hacer con los profesionales fuera

de estas cifras creo que estamos ahora mismo en un momento fundamental la llegada del otoño la gripe estacional esta segunda ola del virus y creo que es el momento que además de la campaña de vacunación de la gripe que ya ha comenzado y queremos impulsar y queremos acompañar creo que el incremento de test y de personal

se pueda llegar a un acuerdo en este tema eskerrik asko eskerrik asko

diferentes administraciones públicas y especialmente aquellas que tienen competencias en la materia es evitar la propagación del virus y evitar también los focos de transmisión detectar sin duda a los asintomáticos aquellas personas que están contagiadas que no dan en apariencia síntomas

y por lo tanto evitar las cadenas de transmisión comunitaria

como se ha dicho aquí las cadenas de contagio siempre hemos defendido y así también lo hemos puesto de manifiesto en las iniciativas que se han podido debatir

de estos meses en la diputación permanente del parlamento porque estaba disuelta la cámara por la convocatoria de elecciones del lehendakari

especialmente a todo el personal sanitario personal de residencias a personal especialmente vulnerables y también la oportunidad de hacer

con un criterio de estratificación de la población hemos conocido como se ha dicho aquí que se ha decidido por parte del gobierno vasco

barrio de sansomendi en donde bueno pues el índice de contagios supera la media

cuando la media es de ciento dieciocho desde luego son lugares

muy alta por habitantes sabemos también que cuando volvimos del periodo vacacional y empezaban las clases

en euskadi la nueva consejera todavía no tenía responsabilidades

puesto que todavía no se había obviamente conformado el gobierno pero

ese momento fue especialmente crítico y nosotros también hicimos un llamamiento a la realización

en aquellos municipios en los que se empezaron a producir contagios que se correspondían con momentos de ocio y de fiestas y momentos de ocio

joven como pudieron ser en los municipios de ordizia eibar

entre otros yo quiero volver a repetir y yo lamento también y lo tengo que decir aquí que

crucial importante por parte de los grupos que apoyan al gobierno ya sabemos todos que tienen mayoría y es algo que sistemáticamente la vamos a ver en esta legislatura pero creo que estamos hablando y vuelvo

las palabras del lehendakari a la unidad al acuerdo en momentos críticos pues creo que tienen que haber por parte de los grupos que apoyan al gobierno y el propio gobierno más gestos en esa dirección desde el grupo partido popular ciudadanos también lamentamos que no se haya trasladado a los grupos con representación en el parlamento señora consejera y yo creo que aquí bueno pues la cortesía parlamentaria creo que hay que mantenerla que hay que tenerla

parlamentaria no ha tenido conocimiento creo que también aquí la señora ubera ha hecho

hayan tenido acceso a ese documento antes que este parlamento donde estamos representados el conjunto de la ciudadanía vasca yo creo que usted tiene nuevas responsabilidades y

puede marcar pues una forma de actuación del equipo que usted va a dirigir y creo que estas formas

en relación al respeto que merecemos los grupos políticos con representación en esta cámara que representamos a la ciudadanía vasca y más cuando continuamente por parte de los distintos miembros del gobierno por parte del lehendakari a la cabeza el otro día también el señor ortuzar apelaciones al diálogo al acuerdo en momentos tan cruciales

muy afectados hay personas que se están siguen contagiando

drásticas en nuestra economía bueno como no me queda mucho tiempo y dicho esto y espero también señora

su relación también con los grupos parlamentarios yo también y como responsable del área sanitaria también pues bueno pues nos gustaría también que al margen de su comparecencia en el parlamento también tengamos oportunidad

de estas cuestiones con usted y con el departamento que usted dirige y también pues que tenga esa deferencia con los grupos

en ese sentido tenemos que decir que otra vez pues la enmienda de los grupos que apoyan al gobierno es continuista simplemente además hace referencia

la noticia de realizar esos cribados máximos de forma aleatoria pues ha saltado ahora creo que es también pues muy poco ambiciosa para bueno pues la situación que estamos viviendo y la que hemos

con un foco que ya ha sido corroborado que entró a nuestro país a españa

aparte de decretar la del decretar la situación de emergencia sanitaria o sea también

de alarma posteriormente también una nueva situación de emergencia sanitaria pero también quiero recordar aquí y voy acabando que yo este grupo vamos el grupo popular y ciudadanos pues esperábamos algo de autocrítica no a la hora de abordar una iniciativa de esta envergadura

que en un futuro se pueda aprender de los errores que hemos tenido demasiada improvisación demasiados cambios de criterios

señora consejera y desde su nueva responsabilidad pues esperemos que usted

porque daba mucha tristeza ver a la anterior consejera la señora murga ni siquiera acompañada por el director de osakidetza o cómo se prescindía absolutamente

especialmente creado y constituido para abordar situaciones de estas características hacía referencia a cambios de criterios

demasiados bandazos protocolos que también variaban y así nos lo han hecho llegar los diferentes responsables sanitarios y que trabajan en primera línea en relación

pues la situación en ese sentido ha sido dramática y nosotros también

el personal sanitario al personal que ha trabajado en primera línea atendiendo

esenciales en nuestra iniciativa nuestra enmienda de totalidad hacemos referencia a que obviamente se haga la realización de esas pruebas los pcr las que sean necesarias en los centros educativos

y finalmente y voy acabando señora presidenta creemos que hay que mejorar todo lo que tiene que ver con los mecanismos de seguimiento de los contagios contactos y brotes del virus

autónomas que también aquí se dejen cuestiones de signo partidista al margen y que obviamente se pueda aprovechar los servicios de las fuerzas armadas
que está proporcionando un servicio eficaz en lo que tiene que ver al equipo eskerrik asko de rastreadores besterik gabe eskerrik asko

presidenta buenos días ya ha explicado la proponente de euskal herria bildu cuáles eran sus propuestas las que planteaba en relación a la estrategia para la detección rápida del virus y más allá de que hoy no estamos ante la misma situación que vivíamos el veintiocho de agosto en euskadi

yo creo que sí hay que poner sobre la mesa las acciones que se han venido llevando a cabo en esta cámara y también por parte del gobierno vasco y que seguramente en algo habrán sido determinantes e importantes para que la situación sanitaria haya evolucionado a una situación de mayor control y eso no es autocomplacencia eso es principio de realidad centrándonos en las pruebas pcr y test rápidos a la población a mí me parece interesante

la diputación permanente del parlamento vasco adoptó el acuerdo de instar al gobierno

y a adoptar las medidas necesarias para evitar la propagación del virus

para una desescalada con las suficientes garantías sanitarias en colaboración con los diferentes agentes públicos y privados aunando esfuerzos

el pasado veinticuatro de septiembre y con relación a las medidas a adoptar para hacer frente al covid

aprobamos entre otras medidas instar al departamento de salud a adecuar y formar a los equipos de recogida de muestras de pcr de rastreadores auxiliares de enfermería

y demás personal que está realizando el seguimiento de los contagios y de los contactos de las personas contagiadas para que se pudiese realizar una atención eficaz y adecuada

elkarrekin podemos izquierda unida nos plantean la constitución de un cluster además de resultar una novedad la propuesta porque no estaba ni en la iniciativa original

en la enmienda de elkarrekin podemos izquierda unida yo lo tacharía de improvisación y a mí me parece que no están las cosas como para improvisar

que revienta y que ahora nos vamos a inventar una mesa de trabajo para investigar para grupos que podrían ser cuatro oiga y ocho y dieciséis y por qué no catorce es que

y que en fin que esto se hace para aportar pero caramba no andemos como pollo sin cabeza es decir planteemos las cosas en los sitios donde hay que plantearlas

donde hay que plantearlas y hagamos el desarrollo y luego critiquemos al gobierno si coge o no la idea pero

que encima no estaba ni en su iniciativa original y que ahora pues porque habrán tenido no sé qué contactos y les habrá llegado el tema ahora lo lanzamos y venga es el gobierno

y no quieren actuar en favor de para evitar los contagios

no se juega así al menos los socialistas vascos no vamos a jugar así

cuenta además con organismos el consejo asesor y la comisión técnica

en dos comisiones en dos consejos precisamente modificando lo que era el plan bizi berri

y eso lo hacen para una mayor operatividad y para que además todos estemos más seguros y haya ese mayor control por parte de los expertos en una comisión técnica que no está cerrada que además

a las reuniones y a esa propia comisión expertos que se consideren del ramo por lo tanto no estamos ni desasistidos ni desprotegidos yo empezaría por ahí porque esto de la alarma a la población a mí me parece que es demasiado serio

autoexigencia pero ser también responsables de lo que estamos planteando en el acuerdo de gobierno además se plantea que en colaboración con el sistema de investigación sanitario

y el desarrollo del tejido empresarial vasco relacionado incluso con equipamientos y con servicios sanitarios para dar una mejor respuesta a las necesidades del sistema sanitario

cómo llevar a cabo sistemas de investigación de innovación y de actuaciones en trabajos comunitarios eh en trabajos de esos colaborativos en cuanto a los demás puntos de esa enmienda transada más centrado en lo que es propiamente las pruebas de pcr y test rápidos los socialistas vascos y nacionalistas vascos les hicimos

que va más allá de la enmienda que hemos registrado y que es la que se va a plantear a votación y como digo era una propuesta que iba más allá

en base a la situación epidemiológica de cada momento y dando respuesta también a lo recogido en el plan bizi berri se sigan realizando cribados masivos en aquellos municipios en los que se detecten

en los que fuera necesario para la detección de personas asintomáticas a fin de poder detener la cadena de contagios y la propagación del virus y les proponíamos también

están hablando de tres puntos en su enmienda transada que nosotros les proponíamos acordar les proponíamos

entre los profesionales perdón entre las profesiones más expuestas al virus y garantizar la suficiencia de personal y de los medios materiales

se propone asimismo garantizar la suficiencia de rastreadores para la localización y seguimiento de los positivos y de sus contactos en aras a evitar la propagación del virus dónde está la autocomplacencia dónde está

que les hacíamos para negociar dónde están

acordar en ese ánimo que nos debiera llevar a todos a luchar contra los contagios y contra

nosotros creíamos que con esta propuesta se daba satisfacción a lo nuclear de la enmienda de la propuesta original de euskal herria bildu

consideramos que además que el planteamiento que les hacemos es coherente con todos los planes con todos los protocolos de vigilancia de base científica que se están promoviendo no estábamos inventando nada pero sí que estábamos haciendo una oferta de ir más allá de lo que se estaba planteando en su iniciativa

saben ustedes que estamos a la cabeza de la realización de pruebas al menos hasta el catorce de septiembre que es cuando yo tengo los datos euskadi estaba a un nivel

a un buen nivel de diagnósticos es necesario señalar que esto de los test

y que eso supone un gran esfuerzo humano material

podemos hacer frente a este gasto y yo sí haría una especial

porque supone que la estrategia del gobierno vasco no es una estrategia estática esto va de actualizar adaptar a la coyuntura y a las situaciones que vamos viviendo y ese plan bizi berri segundo propone cinco escenarios

para acometer las distintas situaciones que se vayan dando propone medios de contención del virus propone

aprovechar las nuevas tecnologías lo que se nos va digamos aportando que son los test de antígenos y por lo tanto creo que la estrategia está trazada y lo que hay que hacer es colaborar impulsar más cosas sí por supuesto que sí esto no es el catecismo y aquí no está todo escrito esto no es palabra de dios pero

es que esto no va de que unos señores que no saben de qué va esta fiesta se les ocurre hacer un plan y escribirlo

que se está dejando digamos hasta casi la salud para hacer planes para ir midiendo

cómo está la situación y hacer propuestas para avanzar porque hay algo que nos une a todos

y es parar el virus y es frenar los contagios y para eso no vamos a ahorrar ni esfuerzos ni medios ni humanos ni materiales y económicos eso se ha dicho por activa y por pasiva desde el momento en que estábamos en confinamiento desde el momento que funcionaba la diputación permanente de este parlamento y seguiremos diciéndolo hasta que acabemos con la covid hemeretzi pero no podemos ir de que somos más listos que nadie

estamos utilizando palabras excesivamente gruesas hablando de corporativismo de intereses económicos de seguidismo a madrid

cuando están atajando determinadas coyunturas porque se lo he entendido y si no discúlpeme pero lo que le he entendido es que se estaba haciendo

yo mientras tengan resultados que vayan en favor de esa contención de los contagios y de frenar al virus y poder con esta pandemia pues oiga

datuak dira decía que euskadi está a la cabeza

que se realizan por cada mil habitantes y estamos a la cabeza no solamente a nivel estatal sino también a nivel europeo

pcr en una semana por cada día

tampoco valdría para mucho más si luego no podemos hacer el seguimiento de los resultados de esas pcr y además se detectan muchos asintomáticos

aporta valor y muchos expertos estiman que actualmente en euskadi estamos diagnosticando por encima del setenta por ciento de los casos reales

pero el setenta por ciento señora ubera no me va a negar que es un número muy importante

y siempre hay que ir adaptando protocolos a las situaciones entonces cuando se empeñan tanto en hablar de los calendarios y de los protocolos y de sistematizar es muy complicado porque la situación es muy cambiante estamos continuamente asistiendo a curvaturas de la ola que nos llevan a tomar decisiones no digo de manera improvisada pero es muy difícil calendarizar y protocolizar todo eso y usted lo sabe porque no solamente creo en la gestión del covid creo que en todas las cuestiones de la vida eso es así

europak aldiz el centro europeo para la prevención y control de enfermedades establece ese listón en el tres por ciento gu azken egunetan hortxe gabiltza ehuneko bost

buenos días de nuevo alcaldes consejeros de sanidad presidentes de gobiernos autonómicos

son muchas las personas y administraciones y entidades que insisten en que un problema global como es el covid uno ha de resolverse con planteamientos globales

cincuenta y cinco sociedades científicas en salud ustedes mandan pero no saben

y me quedo con dos puntos muy concretos que es preciso establecer protocolos nacionales y que es fundamental definir criterios comunes sobre prevención manejo de pacientes estrategia de rastreo y recursos socio sanitarios

en lugar de ayudar han contribuido a complicar la gestión de la pandemia con todos los resultados que ya son por todos conocidos en esta ocasión el estado de las autonomías el modelo autonómico ha demostrado una ineficacia fatal

y todos sabemos que testar mucho es fundamental para una buena prevención para un buen seguimiento pero no surgen unas dudas

y que el número de rastreadores no sea el que aconsejan las autoridades sanitarias internacionales o los colegios profesionales

cuando deberían de ser cuatrocientos sesenta personas más cada día haciendo seguimientos de positivos y de contactos

para empezar protocolos muy diversos casi tantos como centros educativos

todas las preguntas hacían referencia en torno al covid qué hacer con un positivo en clase a quién confinar y cuánto tiempo

qué sucede si el positivo es el profesor cómo se evitan contactos en el patio y si tiene sentido evitar esos contactos y después se producen en el tiempo de ocio en el campo de baloncesto de fútbol de balonmano

no parecen interesados en hacer realidad ese plan ese guion común ese modelo vale sí se comprometen a seguir haciendo muchos test donde haya muchos positivos qué menos no sobre todo después de haber visto lo que sucedió en aquellos meses en los que no se hacían tests ni se esperaban en definitiva vox apuesta por los cribados por la realización de cuantos más tests mejor pero sobre todo

de un modelo a seguir nacional y no diecisiete minimodelos autonómicos que acaban como el rosario de la aurora tenemos ahora mismo el caso y el terrible espectáculo que se está viviendo
estas semanas en la comunidad autónoma de madrid una desgracia para todos los madrileños eskerrik asko martínez andrea

bueno después de escuchar las intervenciones como he perdido la esperanza pues vamos a vamos a responder

se ha dicho y hemos explicado que era bastante sencillo en nuestra opinión ponernos de acuerdo en los puntos que se estaban encima de la mesa y luego diré algo sobre la transacción propuesta yo creo que señora corcuera usted

porque el nivel de o al congreso de los diputados mejor dicho en madrid en todo caso

euskal herria bildu desde enero como han dicho qué propuestas hemos hecho desde elkarrekin podemos desde enero qué tono hemos mantenido euskal herria bildu y nosotros desde enero y qué tono y qué propuestas ha tenido la oposición en el congreso de los

la responsabilidad de nuestro grupo parlamentario antes y ahora es superior a hacer política de destrucción con un tema de la importancia que tiene este tema usted ha dicho dos palabras que por lo menos yo no he dicho irresponsabilidad

ninguna de las dos yo lo que he dicho es que hay fuerte tensión sanitaria que es lo que dijo el señor portavoz del gobierno ayer y lo que dicen

otro gran logro de este gobierno la unidad sindical de los sindicatos en sanidad que es hasta aquí hemos llegado

habrá más movilizaciones eso es lo que hemos dicho que hay fuerte tensión y que hay mucho estrés en el personal de osakidetza y luego si la iniciativa es vieja

si se introduce un punto nuevo que desde agosto se ve importante ya que los sindicatos ya que el colegio de médicos y otros organismos están diciendo que no hay colaboración ni diálogo por parte del gobierno

tampoco vale entonces yo lo que igual tenemos que hacer que el grupo nacionalista vasco y el grupo socialista vasco nos enseñen nos ilustren a los grupos de la oposición a ver lo que podemos meter en una pnl o no

dejaríamos de perder tiempo en algunos debates y luego sobre la enmienda propuesta si la proposición inicial y nuestra enmienda se basa en que hay una insuficiencia palpable que lo dicen los datos en el personal que se está asignando al rastreo

al personal de laboratorio y que y vuelvo a decir no lo décimos nosotros sino que lo dicen

haciendo y ustedes dicen de continuar dotando lo voy a decir literalmente para no equivocarme a continuar garantizando la suficiencia de personal y de los medios materiales necesarios para la realización de las pruebas pcr como de los test antígenos si la gente las personas los profesionales que los están haciendo

que es insuficiente pues evidentemente no vamos a firmar algo que dice que es suficiente pero en la proposición que nosotros le estábamos diciendo incluso se quedaba abierto

de personal pero lo que no vamos a poder admitir por nuestra parte es que se nos diga que se está garantizando porque no es verdad que no estemos como en madrid afortunadamente no quiere decir que estemos en una situación idílica por tanto creo que era una proposición propositiva creo que la transacción también iba en ese sentido y que es una verdadera pena

en esta nueva legislatura por parte del gobierno eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

a este grupo le causa cierta perplejidad que se haga referencia y que se apele a la opinión de los expertos

sistemáticamente en la gestión de los primeros meses de la crisis de la pandemia cuando el país vasco y municipios concretos del país vasco

y llenando las estadísticas de mayores contagios de todo

constituido expresamente para las situaciones como las que estamos

por un comité político y se prescindió de ese consejo asesor

señora corcuera cuando estamos conociendo esta semana

pocas cosas causan sorpresa a la ciudadanía pero cuando el consejo de seguridad nacional ya avisa al gobierno de españa antes del zortzim de la situación y dónde pueden estar

y se autorizaron ciertas concentraciones masivas y ciertas manifestaciones

que podían haber evitado muchos fallecimientos y muchas personas contagiadas y esto es así y esto ha sido publicado y esto no ha sido desmentido y esto además está siendo objeto de intervenciones y de iniciativas en el parlamento vasco quiero decir si ustedes

esta información que como digo no ha sido desmentida eso no solo causa perplejidad sino sonrojo al conjunto de la ciudadanía claro dicen

autocomplacencia hombre yo les recomendaría que cambien un poco la autocomplacencia por cierta autoexigencia

esa interlocución a la que ustedes están apelando continuamente distintos portavoces de este gobierno formado por el partido nacionalista vasco y por el partido socialista y que se esfuercen en llegar a acuerdos

en cada una de sus intervenciones miren ustedes hoy aquí

el valor y el peso de los votos para sacar sus enmiendas de totalidad porque ya obviamente no son enmiendas de transacción adelante y con la aprobación de los votos del partido nacionalista partido socialista pero sin duda alguna en esos

que no son ya acuerdos porque ya digo que aprueban sus propias enmiendas de totalidad presentadas a las distintas iniciativas que piensen que iniciativas por lo menos

de llevar en este pleno relevantes como son medidas concretas para la lucha contra el covid y la situación de los centros residenciales ustedes no han hecho apenas esfuerzos para llegar a un acuerdo y a un consenso a una parte de la ciudadanía importante fuera de esos acuerdos y esos consensos y simplemente sus enmiendas de totalidad es la continuidad instamos al gobierno vasco a continuar

ninguna aportación que hemos podido hacer los grupos de la oposición en esta cámara pero ninguna y yo creo que entre todos los puntos que

los distintos grupos con representación en esta cámara en nuestras enmiendas que además yo creo que somos portavoces que ya llevamos tiempo en esta cámara que conocemos los temas que nos preocupamos con estar con las

alguno yo creo que podían recoger y esforzarse un poquito más

consejo en relación al número de recreadores pues hombre les voy a dar un consejo ya sé que no lo van a tener en cuenta pero no escatimen

como les pasó en los primeros meses que desde luego rechazaron

no escatimen la ayuda de las fuerzas armadas que además en este caso está aquí el señor erkoreka también como vicelehendakari

en un escenario como para escatimar ayudas que encima pueden ser muy valiosas y a la administración vasca no le cuestan

cuando podemos tener la experiencia de equipos formados y que pueden aportar mucho valor en la detección

por el tono es que me libero cada vez que me quito la mascarilla la verdad es que una se viene arriba pero vamos a ver

decirle a la señora ubera por qué por qué por qué por qué oiga mire

en esta materia a veces dicen no lo sabemos le recomiendo el programa de calleja con fernando simón porque creo que es

dice por qué y tiene respuestas y en materia de investigación no puede usted decir que no se está investigando que el gobierno está fuera

porque no es verdad porque además está en el programa de gobierno y está en el acuerdo de gobierno por lo tanto señora ubera se investiga sí otra cosa es que usted venga aquí con una novedad

y la verdad es que cuando usted plantea el clúster hay que decir hombre no es por la palabrita en sí pero es que usted lo plantea de una manera improvisada sin tener en cuenta absolutamente en

es decir usted viene aquí plantea en una enmienda de transacción vamos a hacer un clúster

y así no pueden ser las cosas o al menos yo creo que no pueden ser así otra cosa es que usted considere

yo creo que no si realmente queremos cumplir objetivos acabar con esta pandemia acabar con estos contagios no pode ir improvisando por la vida

y haciendo planteamientos serios y equivocarnos claro que sí claro que nos equivocaremos pero no podemos ir de buenas a primeras sin haberlo tenido en cuenta en su primera iniciativa oiga y lo lanzamos y ahora el reto para los grupos que sustentan al gobierno pues no yo no le he negado

respetuosa lo que le digo es que me parece que está improvisando en este caso simplemente eso no falta de respeto se hablaba de que bueno yo he tachado de irresponsables de la alarma no no

es que este gobierno actúa a base de golpe mediático

de vitoria gasteiz porque hoy teníamos un debate en el pleno oiga así se ha dicho entonces

con esa irresponsabilidad ni los grupos que sustentamos al gobierno estamos dispuestos a asumir esa irresponsabilidad porque francamente pensar que se moviliza toda una población de una localidad y a toda una población de una zona de vitoria

para decir que esto es un golpe mediático a mí me parece que si no es porque la situación fuera tan grave me parece que era de verdad para ponerles a ustedes en fin

de chistes mal hechos señor martínez zatón

eh esto no se trata de formación y hay que venir aprendido y ustedes saben perfectamente que fuera de su estrategia de ir contra el gobierno vasco y de ir contra los grupos que sustentan al gobierno pues la única manera que tienen es que si nosotros les ponemos tres puntos que abarcan cuatro de los suyos

grupos no quieren no quieren negociar porque las propuestas que les hacíamos en esa propuesta de transacción de negociación iban más allá de lo que vamos a votar hoy iban más allá y además es que era un compendio de lo que ustedes estaban planteando

es su estrategia están en su legítimo derecho pero no vengan diciendo luego que vamos con el rodillo que no planteamos alternativas porque las alternativas están muy claritas expuestas y señora garrido vamos a ver cambie usted de medio de comunicación de lectura

que lo de la teoría de la conspiración del zortzim con el tema de la manifestación del día de la mujer

de verdad actualice los datos porque es que eso ya no existe ahora bien si usted sigue con los suyos diciendo voy a leer lo que me interesa oiga pues usted misma pero se va a llevar

continuar por ese camino de verdad porque estamos hablando de algo muy serio y eso está absolutamente ya fuera de toda discusión fuera de toda discusión

de la oposición y señora ubera como creo que nos vamos a ver en muchas más iniciativas yo espero

que de verdad cuando se puedan ir desarrollando iniciativas acciones de gobierno sus propuestas seguramente

de gobierno estaremos encantados de poder negociar gracias eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak berasaluze andrea zurea da hitza

martínez y señora garrido la verdad es que sus primeras intervenciones han sido un absoluto batiburrillo yo no sé sé si no sabían que veníamos a hablar de pcr pero no he oído de ninguno de los dos ninguna propuesta

la estrategia de detección del covid en euskadi han hablado de muchísimas cuestiones pero de lo que se venía a debatir hoy no he tenido

no les he oído ninguna propuesta a usted señor martínez justo ha hecho mención de la enmienda de transacción a la que ha llegado

pero poco más he oído de elkarrekin podemos como propuesta para mejorar en la detección y rastreo de los casos positivos de covid y señora garrido a usted lo mismo ha sido una intervención no sé si

del pleno de hoy y este lo ha traído así un poco más con hilvanes pero la verdad es que propuestas ninguna solamente le he oído otra vez ofrecer al ejército y le puedo decir que como portavoz del grupo nacionalista no necesitamos al ejército español para llevar adelante la estrategia

eguerdi on legebiltzarkideok la verdad es que si hace

diez años a mí me hubieran dicho que en un mes de agosto del año dos mil veinte juan carlos de borbón iba

de celebrarlo iba a estar prácticamente pidiendo que debería de volver pues no me lo hubiera creído pero así es porque pensamos que entre otras cosas huye de la justicia

la huida de juan carlos de borbón es el último episodio de una

por miembros de la casa real en los últimos años actos faltos de la más mínima ética

o representación pública y en muchos casos además actos claramente delictivos que la justicia siempre se ha negado a investigar amparándose en una supuesta inmunidad que se ha interpretado de forma tan extensiva que finalmente se ha convertido en impunidad

la monarquía en nuestra opinión ha vuelto a demostrar que no está a la altura para ostentar la jefatura en el que vivimos en vez de actuar con transparencia y ejemplaridad el rey emérito se despachó el pasado mes de agosto con una nota antes de largarse nada más y nada menos que a un país tan ejemplarmente democrático como los emiratos árabes unidos

fuera del matrimonio o por haber sido víctimas de violaciones hasta el tipo de huida de juan carlos de borbón es execrable

juan carlos y abro comillas tiene todo un entorno de amistades

pues nadie desconoce que es un lugar donde para él el lujo estará al alcance de la mano y a niveles superiores que en muchos otros sitios y un país esto lo añado yo donde a nadie se le escapa tanto sus amistades como la falta de libertad de prensa o falta de libertades políticas

el rey emérito salió corriendo sin dar más explicaciones a una ciudadanía cada día más perpleja y asqueada mientras que importantes fuerzas políticas

intentan construir una especie de cordón sanitario para blindar a la monarquía y justificar lo que en nuestra opinión ya es injustificable más si cabe cuando se produce en el contexto de la gravísima crisis sanitaria y económica que estamos viviendo los partidos integrantes de nuestra coalición

del estado facilitadas pensamos por un marco constitucional

que confunde la inviolabilidad por actos de estado con la impunidad más absoluta para la realización de cualquier latrocinio todo amparado

que ha permitido el enriquecimiento inusitado de juan carlos de borbón especialmente doloroso también en nuestra opinión cuando se ha dado de forma paralela

dos mil ocho la huida de juan carlos de borbón coincidió con la primera investigación abierta en españa apenas

los mismos delitos que ya viene investigando la justicia suiza se trata de hasta siete delitos relacionados con actuaciones presuntamente corruptas y fraudes a la hacienda pública hasta que los tribunales de suiza no han abierto una investigación judicial

para dar la impresión de que se investiga algo más bien todo lo contrario en el año dos mil dieciocho

arbitrariamente la querella por corrupción presentada por la asociación de abogados de izquierdas el partido comunista de españa

por los mismos hechos exactamente por los mismos hechos que ahora

la justicia suiza la imagen dada por un ex jefe del estado que durante sus años de ejercicio institucional ha acumulado una inmensa fortuna es inaceptable para la mayoría de la gente y es inaceptable para la mayoría de la gente

en este parlamento igualmente una justicia merecedora de tal nombre debería actuar para evitar que ninguna persona pueda sustraerse

máxime cuando se trata de la institución que ostenta la jefatura del estado las actuaciones de la casa real evidencian en nuestra opinión que la monarquía es una institución anacrónica e incompatible con la democracia planteaba hace una semana en este mismo parlamento el lehendakari que había que republicanizar la monarquía eso créanme ya se ha intentado sin éxito en este país

a esta parte la monarquía ha representado y representa las garantías que a través de la sucesión en la jefatura de estado se dieron las oligarquías políticas y económicas del franquismo

de fuerzas favorable en un momento complicado para este país hace cuarenta años se nos dirá que en europa hay otras monarquías parlamentarias pero en ningún país europeo la jefatura de las fuerzas armadas está sustraída al control civil y a la voluntad electoral mediante su asignación a un rey en españa

al cual nunca se le puede revocar ni cambiar no existe mecanismo constitucional alguno por el cual se pueda exigir responsabilidad al jefe de las fuerzas armadas

institucional no elegible ni refrendado desde que fue designado por el dictador

si además esa monarquía carece de los mínimos valores éticos exigibles antepone el lucro personal al interés común

y es incapaz de mantener la neutralidad que le exige la propia constitución la conclusión desde luego para nosotras es evidente no tiene utilidad alguna

en las condiciones de vida de una mayoría social por eso pensamos que el debate entre monarquía y república ya está en la calle y está en la sociedad

pensamos que no se puede seguir negando el debate social sobre el modelo de estado con argumentos y justificaciones de otro siglo y de otra época política nosotros

por eso entre otras cosas apoyamos el trabajo de diversas plataformas en defensa de una consulta popular sobre el modelo de estado pensamos que una democracia no puede ser completa mientras la ciudadanía no pueda elegir la totalidad de las instituciones representativas

como pensamos que debe ser en democracia algunos es verdad defienden la legitimidad de la monarquía por su supuesto papel estabilizador en la transición

ese papel si existió desapareció y perdió cualquier función de neutralidad y mediación institucional al tomar partido abiertamente por las posiciones de una parte de la ciudadanía

ocasiones ese papel si existió

de los cuales los que han provocado la huida de juan carlos de borbón son solo el último capítulo conocido la constatación por toda la ciudadanía de la inmensa corrupción que rodea desde hace tiempo a la casa real nos sitúa ante una evidencia inaceptable en democracia la monarquía ha estado y está

y legal algo que no ocurre con otras jefaturas de estado en países democráticos en esta tesitura décimos que es obsceno seguir confundiendo la defensa de la monarquía y la casa real con la defensa de la democracia y utilizar para ello como argumento el supuesto papel de juan carlos de borbón

la democracia la trajo el pueblo y en especial la clase trabajadora y los sectores sociales que mantuvieron la resistencia antifranquista durante los cuarenta años de dictadura

que heredó la jefatura del estado como legado político y por decisión de un dictador independientemente del papel que jugase o no jugase juan carlos

la opción republicana diversa pero mayoritaria claramente entre la ciudadanía vasca es una cuestión de profundas creencias democráticas y no descansa en una animadversión a una familia o a una persona que ostente la jefatura

posicionamientos políticos como el que planteamos hoy a la consideración de las y los parlamentarios vascos son expresión del sentir mayoritario de la sociedad vasca a elkarrekin podemos izquierda unida no nos cabe la menor duda de esto y creo que lo sabemos todas y todos en este parlamento nuestra iniciativa pretende que el parlamento vasco se exprese en unos términos que son absolutamente mayoritarios en la sociedad vasca

y encuestas este mismo domingo un programa especial emitido por etb

y ponía de manifiesto la coincidencia de la opinión pública con los elementos que se recogen en nuestra proposición no de ley original y en la transacción a la que hemos llegado con el grupo el único grupo enmendante el grupo eh bildu al que

a la negociación elementos de transparencia de justicia y de censura de los privilegios por razón de sangre

y esto es lo que proponemos expresar al parlamento vasco si nuestra iniciativa no prosperase cada grupo parlamentario cada partido político representado en esta cámara sabrá cómo explicar a la ciudadanía vasca su posición

que es un fiel reflejo de lo que piensa nuestra sociedad y por eso lo traemos a esta institución para terminar yo entiendo perfectamente la posición contraria y el voto contrario de aquellas y aquellos que en esta cámara se consideran o se consideren monárquicos monárquicas declarados

no comprendo tanto la posición de aquellas y aquellos que desde una tradición republicana siguen creyendo que el posible papel de juan carlos de borbón en la transición es razón suficiente para tener congelado su republicanismo y para seguir defendiendo el sistema monárquico

y lo lamento porque el objetivo de nuestra coalición con este tipo de propuestas no es confrontar

sino convencerles convencerles porque creemos que ese es además el sentir de sus bases de sus votantes de sus afiliadas y afiliados por eso

la visión que se pueda tener del papel de juan carlos de borbón en la transición en este debate lo que décimos es que pasados cuarenta años

a decidir y que nosotras y nosotros apostamos por un modelo republicano pero sobre todo apostamos

la monarquía en este país ha estado blindada no solo a través de los medios de comunicación en la opinión pública sino también a través de la judicatura

chicharro jaunak esan du hitzez hitz acaso no es la monarquía

y qué campechano además súper campechano como en la que sería

qué natural qué natural resultó cuando nos saludó así

aún con su buena educación es como la gente es como la gente

señor lesmes pero bueno cómo no vamos a querer la independencia cómo no vamos a querer construir una república vasca díganme cómo no y la solución no es republicanizar la monarquía como dice

quien defiende que las monarquías solo persistirán si se republicanizan por paradógico que parezca y como decía el periodista iker armentia en redes sociales lo que propone viene a ser

pero la cuestión es que si innerarity fuera asesor del rey quizás

sin embargo llama mucho la atención que el lehendakari de este país que mayoritariamente rechaza la monarquía española esté dando ideas precisamente

buenos días de nuevo a todos no voy a sobreactuar y no pretendo trasladar a la opinión pública un supuesto monopolio de vox a favor de la monarquía

es patrimonio de todos los españoles tanto sean de izquierdas como de derechas ese liderazgo constitucional ha dado como fruto la mayor etapa de desarrollo económico y social en la historia moderna de españa somos la quinta potencia económica de la unión europea la catorceava del mundo

segundo en hispanoamérica nuestra esperanza de vida de ochenta y tres años es una de las más altas del mundo según la ocd y somos un referente en calidad de vida

y nuestra mortalidad infantil es del dos coma siete por cada mil mientras que la media en la unión europea es del tres coma cuatro por cada mil en todos estos datos

en la españa democrática el señor felipe gonzález decía ha sido impecable

nada que reprochar nadie niega que hay muchas cosas que mejorar la independencia judicial

una estructura institucional elefantiásica impagable diría yo en la que sobran miles de políticos y algo que para vox es fundamental y lo más urgente creer en nuestro país estoy convencida de que el grupo político que ha traído esta propuesta al parlamento

sino que lo que pretende es utilizar una incipiente investigación judicial para cuestionar el régimen de mil novecientos setenta y ocho

bildu heredero de eta con todo el hedor de sus asesinatos secuestros y extorsión insulta a nuestra inteligencia pretendiendo darnos lecciones de ética a los demás con toda seguridad a todos los grupos de esta cámara nos gustaría cambiar aspectos concretos de la constitución u otra pero la diferencia es que nosotros lo queremos hacer usando los cauces que propone la propia constitución es decir desde dentro mientras que ustedes señores de podemos dan credibilidad a un comisario sinvergüenza y a una profesional de las relaciones públicas y de los lobys internacionales utilizando las cañerías más sucias del estado

a los que reclaman más participación democrática quisiera darles algunos datos

siete de carácter autonómico ocho veces al parlamento europeo quince elecciones al parlamento autonómico once elecciones municipales doce elecciones provinciales

intermunicipales dicen que la monarquía no se ha votado pero no es cierto la constitución tuvo el respaldo del ochenta y ocho coma cincuenta y cuatro por ciento de los votantes en álava fue del setenta y dos coma cuatro en guipúzcoa sesenta y cuatro coma seis y en vizcaya pese a la baja participación el voto fue del cuarenta y dos

la participación fue del cuarenta y dos coma cinco por ciento cifra bastante similar a la de los ciudadanos que participaron en las últimas elecciones autonómicas del doce de julio por lo cual ojo con cuestionar la legitimidad estamos ante una operación de acoso y derribo al jefe del estado que tiene su inicio el día tres de octubre de dos mil diecisiete

que garantizó el orden constitucional frente al secesionismo de cataluña porque señores la constitución

gracias presidenta consejero señorías bien

obsesiones segunda parte de las obsesiones del grupo proponente de elkarrekin podemos otra iniciativa improductiva alejada de lo necesario manipuladora y distorsionadora de la realidad otro producto del odio de la animadversión y de una concepción rupturista de nuestra sociedad

reciente ahora la iniciativa resumida pero en cualquier caso le ha servido muy bien señor hernández aprovechada aprovechada

destituir al rey derribar al rey pero con mira telescópica aprovechada por ellos

hay que ser muy serio y hay que plantear los debates cuando corresponden y donde corresponden tampoco en una cámara autonómica que no tiene competencias para

el ámbito judicial y el ámbito del cambio constitucional está bien claro que

diarios y hablamos de estas cuestiones que les van a dar a los ciudadanos más problemas y más desasosiego desde luego vital y además

consejos vendo y para mí no tengo a dar lecciones ahora a sin mirar a casa mire a su casa mire en el punto primero de su iniciativa hoy hay una modificación podía haber una modificación o de la transacción de lo de su iniciativa otra posibilidad

el parlamento vasco insta al gobierno vasco a retirar el título de vicepresidente y tratamiento de excelentísimo

este señor sí que está siendo investigado por la justicia por denuncia falsa por revelación de secretos y por delitos

o sea que no sabemos qué ocurrirá pero hoy el rey juan carlos no está siendo investigado por la justicia española ni ha huido puede ir donde quiera y puede volver cuando quiera así que no manipule su situación en este momento desde luego mi grupo no tiene una posición favorable como usted pretendía en su enmienda

ni desfavorable a la actuación de los tribunales ahí están los jueces y si actúan lo harán en función de las causas que identifiquen no porque el parlamento vasco se muestre favorable a instancia de elkarrekin podemos pero el señor hernández sí que dicta sentencias

de todo de corrupción de franquismo de machismo eso vuelve a ser increíble dentro de una iniciativa parlamentaria juez instructor de causas que los tribunales aún ni han puesto sobre la mesa pero el señor hernández sí él instruye la causa y pide al parlamento

una actuación desde luego pues muy curiosa también por su parte y se autoatribuye pues ese carácter de juez

de su iniciativa además de utilizar

para hacer dos cosas que no puede hacer un parlamento autonómico imputar y sentenciar y cambiar la constitución además señor hernández no le atribuya usted al rey funciones

encargos pero es el gobierno el que responde desde luego de las cuestiones algunas de las que se ha referido usted el rey juan carlos ha sido una persona

clave en su reinado se aprobó una constitución sin precedentes una constitución democrática diecisiete estatutos de autonomía

alcanzó económica y socialmente sus mejores cotas entramos en el mercado común nuestras empresas consiguieron

se internacionalizaron e implantaron por todo el mundo y se luchó con dolor y con eficacia contra el terrorismo

el propio rey juan carlos fue objetivo de la banda terrorista eta

sí señora agirre eso seguro que le gusta a usted más

de su grupo esto no vale para nada no es preocuparse de los problemas de los ciudadanos sino incrementar ese desasosiego que hoy tienen los ciudadanos

estériles e impropios para una cámara de estas características no puede ser no puede ser sobre todo viniendo hoy del grupo que viene hoy precisamente del grupo que viene que a gusto se encuentran ustedes y lo aprovechan otros en ese barro de la confrontación

todo el día removiendo la confrontación

tratando de remover esa política mire si en la primera parte de su

se atribuye esas funciones de juez de instrucción y de fiscal en la segunda se nos vuelve constituyente y soluciona vía pnl el modelo de estado ya lo soluciona usted con el

iniciativa los puntos cuarto y quinto en ese viva la república se presentan como esa obsesiva tendencia

del parlamento vasco a los valores republicanos bueno

pues yo no me comprometo señor hernández no me comprometo señor hernández a la defensa de los valores republicanos aunque se vote por mayoría de este pleno

de la democracia las leyes y el estado de derecho que hoy proclama la constitución del setenta y ocho y lo seguiré haciendo mientras esa constitución esté vigente yo no le digo a usted que tenga que ser

no me diga usted a dónde me tengo que unir o que me tengo que hacer republicano o que tengo que defender

además de su mano sería una república bolivariana

vaya planazo se nos viene encima no o qué valores republicanos tenemos que defender

qué valores odio cunetas persecución religiosa

políticos y sindicalistas destrucción del patrimonio cultural artístico

que hemos conocido que esta sociedad ha conocido son los que tenemos que promover o defender yo me quedo y mi grupo con los valores de la constitución española

esos que le permiten a usted proclamar todos los días el viva la república el vivir con valores republicanos y hacerlo

me quedo yo además ese impulso que usted pretendía también a los valores

entendiendo en su punto quinto que los quería extender a otras instituciones para borrar las referencias monárquicas a los ayuntamientos que usted hablaba en el punto quinto no es decir es esta otra obsesión es decir vamos a ver pues mire a fuerza de retirar coronas

iba a ser una masacre de escudos en casas en edificios en instituciones una masacre de elementos artísticos históricos

quitar las referencias monárquicas a la real sociedad vascongada de amigos del país

cómo tienen que funcionar o cómo se tiene titular a euskaltzaindia que es la real sociedad

vasca mire que funciona también en francia ni siquiera los valores republicanos franceses han sido capaces de quitar a euskaltzaindia que también funciona en francia

o a la real sociedad de fútbol o al real unión mire usted es de irún

antiguo encantado de ser real unión hombre

para el próximo pleno temas un poco más que conecten un poco más con los ciudadanos muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

el señor hernández nos propone hoy una iniciativa con tres asuntos

al rey emérito que sea investigado por presuntos casos de corrupción

que me sorprende esta iniciativa me sorprende que la traiga a este parlamento por lo que a continuación le diré y me sorprende ver también en usted tanta incoherencia junta

como usted bien sabe el título de rey emérito es un título recogido en un decreto ley que se concede previa deliberación por el consejo de ministros y que yo sepa su formación política está asentada en el consejo de ministros no le parece más coherente hacer allí esta propuesta y asumir lo que allí se decida no se siente representado por pablo iglesias por irene montero

para poder defender sus posiciones políticas de esta naturaleza

señor hernández duda usted de la justicia cree que es compatible esa duda con compartir responsabilidades de gobernanza

capacidad para promover actuaciones señor hernández cree usted que si hoy en españa

su formación política se hubiera atrevido a implicarse en la gobernanza de españa

señor hernández su iniciativa pretende impulsar lo que dice en ella

al parlamento vasco para criticar la política de su formación en españa

en el gobierno de españa esta iniciativa ni tan siquiera tiene la categoría de ocurrencia porque ni es graciosa ni es ingeniosa

a la justicia porque en algunos de sus párrafos usa un lenguaje preconstitucional y porque niega la evidencia cuando mediante una afirmación confusa

un partido que gobierna en españa que quiere ser influyente en este parlamento no puede proponernos un conjunto de comentarios coloquiales

en algunos ámbitos para que aquí se conviertan en compromisos con fundamento

no es de recibo señorías los actos cometidos por el anterior jefe del estado de acuerdo a las leyes vigentes están y estarán sometidos a la rendición de cuentas y si en ellos hubiera indicios de delito deberán ser

por la justicia quien de acuerdo a su independencia será quien finalmente resuelva hoy se puede afirmar que las actuaciones del anterior jefe del estado

son conocidas públicamente son motivo informativo por la mayoría de los medios de comunicación y están sometidas cada día a variadas opiniones y valoraciones además de una tarea de la fiscalía que viene trabajando sobre ellas

ha hecho en muchas ocasiones en los últimos meses hablar de la constitución española

con el libro debajo del brazo y dándonos lecciones sobre constitucionalismo pues por lo tanto como ya sabrá gracias a él y a su propio conocimiento

de la constitución la forma política del estado español es la monarquía parlamentaria

reconocida en un texto constitucional consensuada aceptada y no una herencia

el artículo nueve de la constitución señala que los poderes públicos están sujetos a la constitución los poderes públicos su gobierno del que forma parte y yo

y a quien da apoyo político a quien gobierna es decir a ustedes y nosotros que somos los que estamos dando apoyo a ese gobierno

el título segundo de la constitución establece en diferentes artículos cómo ha de funcionar la monarquía y el título décimo establece cómo ha de hacerse también

valores republicanos respecto a esa frase que tanto gusta y tanto se manosea a esa frase que tantas veces se usa

que es tan redonda y no en pocas ocasiones como la que nos ocupa tan hueca tan indefinida y vacía de contenido

le haré algunas apreciaciones le suena a usted democracia

respeto a las leyes participación ciudadana derecho a una salud pública y en igualdad

a una educación pública y en igualdad le suena a usted la insistencia de políticas sociales para corregir desigualdades

existencia de poderes públicos o igualdad ante la ley considera estos como valores republicanos ve o no ve estos valores en el día a día de este parlamento de sus leyes y de los demás parlamentos y leyes en españa

bélgica canadá dinamarca reino unido y también dos muy singulares noruega y suecia

aparecen en todas las evaluaciones internacionales de calidad democrática como el primero y el tercer país del mundo y quizás por ello sería conveniente no mezclar el fuero y el huevo mire yo no voy a defender al rey emérito

ni sobre la ética de algunas de sus actuaciones que las defienda él cuándo y dónde proceda ni tan siquiera voy a defender la monarquía parlamentaria como forma política del estado español sí voy a defender algo más importante

voy a defender el pacto constitucional que no fue herencia de nada que fue diálogo negociación y acuerdo para dotar a un país que salía de cuarenta años de dictadura de represión y de negación de derechos

para forjar un estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico

la igualdad y el pluralismo político un pacto constitucional en el que participaron y acordaron socialistas y comunistas conservadores

y demócratas de conveniencia ese pacto tan transversal tuvo que elegir entre monarquía o república y dictadura o democracia

tuvo que elegir y eligió entre acordar o confrontar

no nacer como algo inmutable sino como algo vivo primero para desarrollarlo y llegado el caso para reformarlo un pacto constitucional que fue refrendado por la ciudadanía y que por lo tanto no es herencia del pasado

aunque esta democracia es tan abierta que también cabe renegar de él contar mentiras sobre él

y acudir a las instituciones y es que a veces la democracia es bella e incómoda eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak

de la unidad de la monarquía constitucional esa es la base del denominado conflicto vasco

los vascos la relación se configura se configura a través de los fueros o los derechos históricos pero vamos más adelante porque yo creía que alguna de estas expresiones de los valores republicanos pues iban a tener también alguna en la enmienda de transacción pero no se dice directamente que este parlamento aboga por la desaparición de la monarquía pero claro cuando vamos a lo que sucedió por ejemplo después del catorce de abril del treinta y uno el diecisiete de abril en concreto cuando los alcaldes

mundaka y elorrio llaman a los concejales

es la guardia civil y el ejército en nombre de la república quien para esa manifestación esa iniciativa

y después del resto de territorios y es justo

después de firmar proclama lo que es el reconocimiento a la república evidentemente

para el pueblo vasco y como fruto de todo ello después

pasaron meses y años pero antes de la guerra civil más de cuatrocientos cincuenta alcaldes trasladaron

a la república y ya vimos lo que sucedió

en plena guerra y un gobierno en plena guerra luego si vamos a los principios que consagraban la posición política de la representación municipal

el año treinta y uno hay dos bases república vasca confederada con las demás repúblicas ibéricas ese es un principio república vasca confederada con las demás repúblicas ibéricas

de euskadi sobre sí misma conjugar los dos principios

también a quien quiere promover los valores republicanos pues igual no le satisface o no está de acuerdo del todo

las leyes abolitorias de mil ochocientos treinta y nueve

y qué fueron las leyes abolitorias si no fueron actos de fuerza

que en todo caso la corona o los reyes tendrán que

en la relación con las instituciones de este país hori da bat

bozkatu dugu hemos votado expresar nuestra posición favorable a que juan carlos de borbón sea investigado judicialmente en el estado español y en su caso sea enjuiciado

en los que estuviera implicado hemos votado también sí a que se constituya la comisión de investigación en su caso que se promueva la investigación

en la mesa del congreso de los diputados el partido popular ciudadanos y el partido socialista impiden

tenga ningún desarrollo entonces lo que no conseguimos allí

con la idea de que vamos a crear una envolvente un cerco de presión al gobierno de sánchez que puede tomar las iniciativas recordaba el señor prieto la semana que viene se puede ir instar al gobierno de españa a retirar el título de rey y tratamiento de majestad a don juan carlos de borbón esto es

del consejo de ministros por qué no se hace allí y se trae aquí horregatik berriz ere aldarrikatzen dut euskal

este es nuestro pueblo y no tenemos rey no sé si se lo van a decir ustedes

que venga a euskadi yo creo que no yo creo que no

yo entiendo el papel que tiene que jugar el gobierno vasco yo entiendo el papel institucional que tiene que jugar el gobierno vasco y entiendo que el gobierno vasco no podría firmar una iniciativa como la que hemos traído a esta cámara perfectamente

del gobierno del estado pero muchas veces nos recuerdan en esta cámara que ustedes no son el gobierno vasco que ustedes son parlamentarios que apoyan y sustentan al gobierno vasco pero que son grupos parlamentarios no son el gobierno vasco y por lo tanto yo no entiendo sabía la posición contraria del partido socialista porque conozco sus posiciones y además

nunca ha sido arremeter contra el partido socialista en esta cuestión porque creo que con el tiempo

abiertamente republicanas por un modelo republicano en el estado español pero no comprendo que ustedes se escuden en determinadas cuestiones

no respaldarla si la iniciativa pide al gobierno de españa como era

este no es el sitio tenemos que ir al congreso o incluso al consejo de ministros yo estoy de acuerdo hay que ir allí pero también aquí se les puede instar

este no es el sitio si pasado el tiempo porque esto fue en agosto tenemos que negociar en este parlamento ante una enmienda presentada por el grupo eh bildu que sí

cualquiera lógicamente y defienden su posición y lo que ellos vienen defendiendo

no están en la iniciativa esa es su posición igual que en la iniciativa no habla nada de la tercera república

defiendo si la iniciativa se transforma en una iniciativa declarativa como lo que finalmente es una iniciativa declarativa como expresión de lo que en nuestra opinión es la opinión mayoritaria de la ciudadanía vasca

yo creo que sí aquí estamos para cuestiones concretas

y estamos para cuestiones políticas más generales porque esto es un parlamento y qué mejor sitio que el parlamento vasco para expresar el sentir mayoritario de la sociedad vasca también sobre la jefatura del estado por mucho que el señor egibar diga que los vascos no tenemos reyes

ya me gustaría a mí que los vascos no tuviéramos en este momento reyes

pero esa no es la realidad a día de hoy y nosotros sí traemos un debate que

al señor barrio pues le parece que no aporta nada este tipo de debates yo creo que sí y creo que su partido

con cuestiones del mismo pelaje sobre otras cuestiones ustedes las llevan también a la cámara y efectivamente me dice que no le diga que se tiene que hacer republicano yo no le he dicho nadie que se tenga que hacer republicano yo he pedido o he traído una iniciativa que pide que este parlamento se posicione en el sentir mayoritario de la sociedad vasca que es

el fin de la monarquía pero no le pido a ningún monárquico que se haga republicano de hecho he dicho en mi anterior intervención que entiendo perfectamente el voto de aquellos que se declaren

lo que no entiendo es el voto de aquellos que desde una tradición republicana siguen justificando y en sus intervenciones creo que lo han demostrado

sobre el papel de la transición para seguir defendiendo la monarquía yo

yo no les cuestiono la posición que tenga el partido socialista

el papel que jugó mi partido el partido comunista precisamente precisamente no solo en el pacto constitucional sino en que aceptásemos que hubiera un rey y también conoce

sobre esa cuestión y nuestra posición actual nosotros lo que trasladamos pensamos es un debate de ahora de ahora porque pensamos que no se puede seguir justificando sobre lo que pasó

que el mejor modelo para un estado pueda ser el modelo republicano o el modelo monárquico por lo tanto nosotros no entendemos eso y sí seguiremos compaginando iniciativas concretas sobre la sanidad

con iniciativas políticas de calado porque vinimos a este parlamento a hacer política no somos técnicos de nada venimos a hacer política nada más eskerrik asko

elkarrekin podemos al señor hernández por su disposición para llegar a un acuerdo

ejemplares por qué se sienten en esa necesidad de defenderlas casi de una forma

por qué son tótems irreformables en los estados democráticos las leyes las constituciones se van adaptando a las voluntades y a los intereses de la ciudadanía

en los estados autoritarios menos democráticos en cambio ocurre lo contrario el marco común se impone con cuál de esos estados se identifican ustedes por qué tienen miedo de preguntar a la gente qué opina sobre el modelo de estado quizás por la misma razón que el cis no pregunta sobre la monarquía desde el dos mil quince

bueno hoy en el punto del día que tenemos hay dos protagonistas el rey emérito y pablo iglesias porque el acoso y derribo que está desarrollando podemos contra la monarquía solo pretende tapar la inspiración de un hombre mesiánico de alguien que no duda en poner en jaque al estado para tapar sus vergüenzas

y que solicita la imputación del vicepresidente por descubrimiento y revelación de secretos daños informáticos denuncia falsa y simulación de delito si pablo iglesias no respeta las reglas del juego ni el marco constitucional no sé qué hace siendo el vicepresidente del gobierno de españa

alguien en esta cámara se imagina a pablo iglesias o echenique como jefes del estado nosotros no desde luego eskerrik asko martínez andrea

tenía razón debate estéril para que los nacionalistas se froten las manos y para que hablen en nombre de todos los vascos como ha dicho el señor

disfrute aún más bildu y la representante de bildu la señora agirre

o sea que ese es el debate que usted pone en la mesa que usted tira la pelota y algunos la rematan o sea que en ese sentido pues eso es la esterilidad del debate y el señor egibar

somos el reino de españa señor egibar aunque a usted le pese

pero el pnv tiene rey de la misma manera qué haríamos si los alaveses diríamos que no tenemos lehendakari

su rey y eso lo sabe usted perfectamente mire

cómo que no tenemos rey pero menudos codazos se daban dirigentes del pnv constantemente en las inauguraciones de la acería compacta de barakaldo del museo guggenheim del puente colgante y sus reformas

claro que sí claro que sí y además ya usted lo simplifica de una manera muy graciosa utiliza los derechos históricos

las leyes y las vicisitudes que hemos tenido en este país en relación con los derechos históricos

lo que más nos une a los vascos con españa lo que más íntimamente además de una manera más especial que otras partes de españa son los derechos históricos es la foralidad que siempre se ha reconocido por la constitución española y por los reyes de españa o sea que en ese sentido es decir no se puede

lo que esencialmente nos une a las instituciones de españa son esos derechos históricos esa foralidad y esas instituciones nuestras que lo hacen íntimo y que lo hacen estrecho

y a los guipuzcoanos y señor hernández

trata de vincular al pnv con que grupo parlamentario o gobierno

el lehendakari es grupo parlamentario eh y es el más importante de los miembros del gobierno y forma parte del grupo parlamentario

vínculo entre grupo parlamentario y gobierno hay

al final ha dicho que porque como yo le he criticado las cuestiones que traen a este parlamento y le he dicho que esto no sirve para nada que es improductivo que genera crispación

preocupación en relación con estos debates que no van a ninguna parte

presentaremos cosas con las que usted no esté de acuerdo nosotros presentamos cuestiones con las que usted no está de acuerdo pero

dentro del marco constitucional y dentro de lo que prevén las leyes nosotros no pedimos decir que se incumplan las leyes y desde luego

nosotros lo que entendemos y comprendemos muy bien es la división de poderes nosotros no queremos hacer que el parlamento vasco

lo que tiene que instruir un fiscal lo que tiene que instruir un juzgado lo que tiene que analizar ese juzgado quien tiene que estar investigado y quién tiene que estar imputado no señor hernández no nosotros no lo hacemos o sea nosotros no vamos a utilizar a este parlamento

condenen a pablo iglesias por los delitos que ha podido supuestamente cometer no señor no lo vamos a hacer porque hay que tener respeto a la cámara muchas gracias

es que podamos tener debates entre grupos políticos que tenemos una inspiración republicana a mí

porque además falsea la realidad para intentar

y es que ustedes están hoy íntimamente comprometidos con el pacto constitucional ustedes hoy están gobernando con esa constitución han formado gobierno con esa constitución y vienen aquí a provocarnos con un debate

e incluso se le ocurre decir que poco más o menos el rey fue el que hizo la transición en españa

de la transición en españa desde luego no es ni la más importante y

tuvimos mucho que ver socialistas comunistas conservadores

que optamos por una reforma política

a la democracia porque no había condiciones para hacer ninguna otra cosa y porque no queríamos y porque veníamos de unos antecedentes que conocíamos

de la guerra y sabíamos las consecuencias de la guerra civil y porque no queríamos reproducir esto

un pacto del conjunto de la sociedad y del conjunto de las fuerzas políticas para hacer un planteamiento de reforma y para pasar de una dictadura a una democracia y eso se hizo con el pacto constitucional por lo tanto no se hizo ni con quien había

ni con nadie ajeno a reglas democráticas a partir del proceso constituyente y esto usted no lo puede falsear

por historia política propia por historia política de su partido por las fuentes de las que usted ha vivido por la historia del comunismo en españa y no lo puede falsear en la actualidad

en la gobernanza de españa más allá de que tengan posiciones políticas particulares que en su momento si quieren las puedan defender pero en estos momentos

están en la máxima responsabilidad política de este país usted cree que es honesto que es leal que es razonable venir a provocar este tipo de debates donde ya no es que no se tenga competencias porque

sobre las que no tenemos competencias pero sobre las que tenemos incumbencia por supuesto que tenemos incumbencia

sobre la forma política del estado no es ese el

el problema es que usted viene aquí a proponer cosas que sabe que las tiene que hacer en todo caso su propio partido junto con otro más en un consejo de ministros si es que estuvieran por esa posición pero usted sabe que no están en esa posición

para dinamitarlo o sí porque si es no

y por eso ya usted las primeras palabras que le he dedicado han sido me sorprende mucho en usted

no es tan incoherente como la propuesta que nos ha traído hoy aquí no sé si será la nueva dinámica de su grupo

de grupo mañana nos vestimos del gobierno de españa hoy estamos con la ministra de trabajo

si quieren seguir ustedes en ella allá ustedes

a provocar debates de confrontación y luego a lamentarse

que curiosamente estamos gobernando conjuntamente españa vaya papelón que ha traído usted aquí revíselo

sobre la vida del rey emérito que está siendo investigado por delitos ta ta ta hoy onartzen dugula esan diot eta

zera el parlamento vasco aboga por el fin de la monarquía del estado español